gracias señora presidenta buenos días lehendakari consejeros
buenos días a todos mesedez isiltasuna y sobre todo buenos días a quienes hoy nos acompañan

y que son los protagonistas de esta ley porque gran parte del esfuerzo para que esta ley se apruebe y parte de las aportaciones han sido suyas la seguridad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas como tal viene recogido en nuestra constitución y el artículo ciento cuatro

el estado por tanto está obligado a garantizar ese derecho por lo que desde nuestro grupo abogamos por una policía como servicio público una policía cercana

en euskadi el texto del artículo diecisiete del estatuto de gernika establece las funciones generales atribuidas

en aplicación de este artículo se aprobó la ley de mil novecientos noventa y dos cuya quinta modificación hoy aquí debatimos y vamos a aprobar una ley que supone

del servicio activo modulado en la segunda actividad una ley que pretende una adaptación de la normativa a las exigencias actuales

a los nuevos retos de delincuencia que hoy existen que no son iguales a los de hace diez años ni siquiera a los de hace cinco

que haga efectiva esa exigencia de una policía para el siglo veintiuno cercana a los ciudadanos garante de los derechos humanos y sociales del cumplimiento de la ley y una policía coordinada

ese es el modelo de nuestras policías lo que le da

les hace estar en un lugar preferente entre las instituciones en las que confían los vascos y

es una oportunidad para reforzar y mejorar ese modelo y de mejorar el marco jurídico que regula los distintos aspectos de los profesionales de la policía vasca

y que no ha sido posible vamos a ver si a la tercera va la vencida algunos hablaban a propósito de la enmienda de la totalidad del modelo

y policial restringido al concepto de seguridad ciudadana y de criminalidad y algunos apelaban a que algunos comparecientes habían dicho eso y llama la atención que para lo que les conviene apelan a las manifestaciones de los comparecientes

no apelan para otras sus peticiones son simplemente reivindicaciones corporativistas pues bien en primer lugar como he dicho antes nosotros creemos en el modelo de nuestra policía necesario mejorar perfeccionar actualizar sí pero creemos en el modelo

que hace el departamento de ese modelo la organización cómo lleva a la práctica el modelo como dijimos a propósito del debate de las enmiendas a la totalidad la organización tiene mucho mucho ámbito de mejora como hemos puesto de manifiesto muchas veces en esta cámara y lo vamos a seguir haciendo porque muchos de los que han comparecido en esta cámara han señalado que la organización

en la gestión de policías locales etcétera por lo que se hace necesario un replanteamiento de la organización pero eso no es cuestión del modelo como digo eso es cuestión de

ese modelo pero si atendemos a lo puesto de manifiesto por los que han comparecido en la comisión de seguridad para dar su opinión sobre esa ley si para todo vamos a tener

también debiéramos de tener en cuenta que la inmensa mayoría puso sobre la mesa la necesidad de que la ley se aprobase de que se diera el pase a la quinta modificación de la ley de policía desde nuestro grupo se lo preguntamos directamente a los comparecientes

o la inmensa mayoría dijeron que sí y ese es el ánimo con el que nuestro grupo empezó las negociaciones desde el primer momento

algunas de las cuestiones que hemos planteado vía enmienda porque en esas comparecencias nos pusieron de manifiesto una serie de cuestiones a mejorar en esta ley

son las que han servido a este grupo para llevar a cabo muchas de las enmiendas presentadas aunque con ello algunos nos califiquen como los representantes parlamentarios de los sindicatos policiales y a este respecto quiero hacer un inciso porque algunos grupos nos tienen acostumbrados

las demandas de los trabajadores de muchas empresas de los trabajadores de la administración a hacerse eco de sus reivindicaciones ahora bien cuando esas demandas provienen de la policía local de la ertzaintza de los alguaciles entonces qué sucede se descalifican esas reivindicaciones y se dice que solamente hacen una defensa corporativista por qué

y se ve al policía por esa visión de prejuicio que algunos tienen sobre la policía porque si no no se explica

que tienen complementos reconocidos desde el año dos mil doce los funcionarios de nuestra policía aquí cuando lo reivindican se le dice que lo que están reivindicando son prebendas

para realizar nuestras enmiendas en dicha ley se han aceptado

de nuestras propuestas propuestas relativas a garantizar más la independencia de la comisión de control y transparencia a una mejor regulación de lo relativo a la salud y seguridad laboral a la disminución de las sanciones y de los tiempos de prescripción

a una mejor ordenación de la formación a la regulación de la regulación de puestos de trabajo

designación que no podrán superar el siete por ciento del total y el seis por ciento en la escala básica e inspección de manera conjunta medidas

aumento de la edad de ingreso a treinta y ocho años y que se computen los años trabajados en la policía municipal

enmiendas con relación al cuerpo de alguaciles con el fin de resolver la cuestión

para dar legalidad a sus funciones otorgándoles la categoría que les corresponde y su definición como agente municipal con relación al uso del arma por parte de la policía municipal hemos

obligación que viene refrendada por la jurisprudencia la sala de lo contencioso administrativo del tribunal superior de justicia del país vasco señala que la realidad social nos demuestra que la seguridad

en grado tal que el uso de la fuerza y más exactamente de armas de fuego se convierte en imprescindible bien para mantenerla bien para restaurarla no tiene sentido a nuestro juicio que un policía local

ejerciendo la misa función de orden público y estén en desigualdad de condiciones

armado y por lo tanto debe poder contar con armas hemos también introducido la obligación de que la administración indemnice a los agentes por la lesiones sufridas en acto de servicio cuando los culpables sean insolvente y hemos dado

reclamaron judicialmente y en virtud de una medida cautelar culminaron el proceso en la academia incluso algunos llegaron a realizar las prácticas pero fueron expulsados en virtud de una disposición final introducida

y sí hemos introducido la regulación de la carrera profesional de la ertzaintza porque creemos que es de justicia se firmó en el año dos mil once pero el gobierno en ese momento no lo cumplió

y los sucesivos gobiernos tampoco lo han hecho y en este momento se incluye en una ley y se incluye

largamente demandada por todos los agentes por todos esos funcionarios que necesitan estar en igualdad de condiciones con otros funcionarios y hemos mantenido dos enmiendas relativas al euskera y por qué porque consideramos en primer lugar que los agentes

que el resto de los funcionarios vascos por lo que las exigencias no debieran de ser las mismas

a la hora de distribuir los perfiles lingüísticos en cada una de las comisarias no se tiene en cuenta la realidad sociolingüística de las distintas zonas de euskadi y no se atiende porque en este momento los agentes euskaldunes ocupan plazas en comisarías cuyos municipios su realidad sociolingüística no es mayoritariamente euskaldun

los que logran plazas son aquellos agentes que no están euskaldunizados y con ello lo que se hace es que no se garantizar el derecho de los ciudadanos a poder dirigirse a la administración en euskera

que el resto de los funcionarios para poder euskaldunizarse

por supuesto que ha habido reclamaciones que no se han conseguido en toda negociación siempre hay cuestiones en el debe y cuestiones

satisfechos porque creemos que estamos ante una buena ley una ley largamente demandada que ha sido posible después de muchos acuerdos después de muchas conversaciones después de muchos mails de muchas llamadas telefónicas gracias

gracias a los sindicatos de la policía local

a los sindicatos de la ertzaintza todos ellos con sus aportaciones han contribuido
a mejorar esta ley muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

presidenta señorías hoy es un día importante para la ciudadanía vasca lo es para su bienestar lo es para su seguridad porque la ley que aprobaremos

y sus medios para que en el futuro la seguridad sea de mayor calidad hoy es también un día importante para este parlamento porque moderniza actualiza esta política pública este servicio público hoy es un día importante para los servidores públicos de la seguridad ciudadana porque esta ley atiende y da cauce a demandas profesionales laborales sindicales reclamadas en los últimos años

hoy es un día importante para la política porque se firma se sella un nuevo acuerdo entre diferentes

y pasando a la acción la ley que nos ocupa ha contado con mucho tiempo para la reflexión

hasta darle cuerpo de ley la ley que hoy aprobaremos cumple con todos los retos que nos habíamos propuesto mejora la seguridad de las personas y la de sus intereses

mejora la incorporación de mujeres en todos sus niveles mejora la formación los medios materiales los recursos humanos los recursos económicos de los servidores públicos

ciudadana esta ley ha dispuesto de un año entero para ser estudiada revisada participada y acordada un año intenso en comparecencias

y entre grupos políticos de este parlamento un año para contrastar modelos y experiencias un año que ha ayudado el texto que hoy sancionaremos en la tramitación de esta ley se ha podido observar con absoluta claridad que han existido y existen dos actitudes muy diferentes

pero coincidente en la determinación de que no saliera adelante un bloqueo expresado en sus enmiendas de totalidad y en su negativa a

cualquier enmienda hasta el punto de retirar aquellas sobre las que les habíamos manifestado y ofrecido

otra actitud la conformada por el partido nacionalista vasco por el partido socialista y el partido popular de compromiso con nuestras tareas y obligaciones legislativas de atender a la mejora de los servicios públicos de saber sumar encontrando lugares comunes

que el pluralismo político ideológico programático no fuera obstáculo para trabajar en este parlamento siendo de esta manera útiles a la ciudadanía que representamos en la actitud de bloqueo de bildu y podemos dos titulares pueden sintetizar su posición bildu mantiene

podemos insinúa un nuevo modelo tan idílico como inexistente señorías la quinta modificación de la ley de policía del país vasco camina con paso firme por el concepto de sociedad moderna que tiene la ciudadanía en su mayoría

ética control y transparencia medios suficientes

el resultado de las nuevas aportaciones a esta ley ha tenido en cuenta la necesidad de enfrentarnos a nuevas formas de delitos de participar y colaborar en la seguridad en una seguridad que es global la ley hace suyo el código europeo de ética de la policía

del servicio policial refuerza los estímulos retributivos mejora los reconocimientos mejora la formación y las relaciones laborales la ley avanza en la confianza entre la ciudadanía y la policía proporcionando más mecanismos de prevención y tratamiento de quejas por los servicios

se regula mejor la carrera profesional se regula el régimen de las especialidades para tareas con conocimientos específicos se avanza en la protección social básica en la vigilancia de la salud laboral en la prevención de riesgos laborales

en el régimen disciplinario se proporcionan mejor las sanciones y las garantías de las personas expedientadas se moderniza la regulación de la estructura organizativa de la función de política judicial se mejora la coordinación entre diferentes policías

la figura de los agentes municipales en servicios de policía local y la de agente de movilidad se regula y se mejoran los aspectos señalados y muchos más

el autogobierno sale reforzado porque garantiza

como las contempladas en esta ley sale reforzado porque materializa la capacidad que tenemos en la sociedad vasca para decidir de manera reglada cómo queremos convivir con qué políticas públicas con qué servicios públicos

cuando se usa como es el caso para mejorar y progresar se prestigia el modelo y se muestra su gran potencial

a mucha velocidad y en algunas cosas con imperceptibles fronteras la globalización ayuda a expandir esas cosas

y los delitos con instrumentos modernos convivimos con delitos clásicos con delitos que se trasforman y con nuevos delitos esta realidad

en periodos más cortos de tiempo sea necesario revisar la evolución de las amenazas la calidad de la seguridad y las herramientas necesarias para garantizarla

esta ley quiere ser también un reconocimiento a la policía vasca a su trabajo y entrega esta ley se convierte en una expresión de gratitud a la policía vasca en una expresión de confianza en ellos y en ellas en un modo de decirles que les consideramos unos buenos servidores públicos

en las mejores condiciones señorías libertades públicas y seguridad van unidas en esta ley y por eso hemos querido que la evaluación de la calidad de la seguridad los controles políticos y profesionales la dación de cuentas a la ciudadanía

gracias a quienes han hecho aportaciones para que hoy esta ley cuente con una holgada mayoría parlamentaria y con un amplio apoyo institucional social
y sindical muchas gracias eskerrik asko prieto jauna

especie de simulacro de debate partido nacionalista vasco y partido socialista le dan carpetazo de forma definitiva al diálogo y al acuerdo amplio que nos debemos como sociedad entorno a la seguridad

para la convivencia y para la democracia pero es que además hoy ustedes pretenden sacar adelante con el único apoyo del partido popular

mala para la policía para toda la sociedad vasca y que da

a prácticas que puede que no se ajusten a derecho ya sabemos en estos últimos días que el propio tribunal supremo acaba de zanjar este miércoles una controversia con claridad

no resulta ajustado a derecho el nombramiento de agentes de policía local en régimen de interinidad ante esta sentencia

habría sido paralizar la tramitación solicitar un informe jurídico

y que es lo que ha propuesto elkarrekin podemos ayer mismo pero no parece que van a seguir adelante en un acto

que puede tener consecuencias imprevistas para todos los ayuntamientos de euskadi y para la seguridad de todos los ciudadanos de euskadi esto no es en absoluto responsable para con la ciudadanía vasca y para con las instituciones

este dictamen y poder arreglar este entuerto lege honek kontsolidatu ditzakeelako praktikak

antes de ninguna sentencia la ocupación de plazas vacantes por parte de personal interino es contraria al estatuto básico del empleado público la interinidad ha ido creciendo

interinos la sentencia del tribunal supremo debería ser analizada y contrastada con este proyecto de ley porque puede suponer un

para el sistema de policía local de euskadi que se ha sustentado en gran medida en este tipo de contrataciones en contrataciones interinas y este fallo impacta de forma directa sobre los servicios

en este régimen de interinidad puede tener consecuencias directas en todos los cuerpos de policía local de euskadi pero no solo eso es que afecta directamente a la seguridad de nuestros municipios es que desplazan ustedes la precariedad laboral

y el nuevo texto no aportará medidas para adoptar ni de estabilidad a las plantillas de policía local

a los ayuntamientos para adecuar la plantilla en épocas de mayor demanda como puede ser el verano quién va a cumplir estas funciones ahora porque su nueva figura no sirve para ello o peor van a acabar haciendo esos auxiliares de policía de manera ilegal lo mismo que hacían a día de hoy los interinos

si a día de hoy las plantillas corren el riesgo de quedarse a la mitad o la mitad de sus agentes están fuera de la ley

alternativas para que los ayuntamientos puedan corregir una tendencia que estaremos de acuerdo con que no es deseable para un modelo policial de calidad o ni siquiera estamos de acuerdo en que esto no es deseable para un modelo policial de calidad

que esta sentencia pondría en cuestión diez años para tramitar un quinto parche y qué harán mañana tras la aprobación comenzar la inmediata a redactar el sexto

a abrirla por falta de planificación y por falta de precisión lege proiektu honen

lege honetan ustedes han efectuado un golpe de timón a la derecha en el modelo policial van a aprobar hoy

temas diversos centrales y para realizar este trabajo hemos tomado como referencia buenas prácticas de euskadi recomendaciones internacionales en la materia recomendaciones del ararteko prácticas y modelos policiales existentes y contrastados en grandes ciudades de europa además de mantener reuniones con todos

la ley debe abordar las condiciones laborales de la policía vasca efectivamente sin duda

pero esta ley no puede quedar reducida a ser un convenio con una parte del sector esta ley trata temas fundamentales para toda la sociedad introduce cambios

hemos hecho además propuestas concretas propuestas para avanzar en un modelo policial cercano debidamente formado

orientado a la prevención y a la protección de las personas y el bien común

bilingüe y con condiciones laborales adecuadas transparente y supervisado por los poderes públicos en definitiva que sea un reflejo de la sociedad vasca del dos mil diecinueve y un reflejo de los retos que tenemos

y con más detalle se han inventado una comisión que llaman de control y transparencia comisión que depende del propio departamento de seguridad

cualquiera puede entender que no existe ni autonomía ni independencia para una comisión de estas características esto es un simulacro de control y transparencia que es contrario

el protocolo de estambul o las reiteradas recomendaciones hechas por el propio ararteko

para el funcionamiento conforme a derecho del entramado institucional son ignorados permanentemente y caen en saco roto el texto que han pactado

y desarrollo profesional en los diferentes cuerpos de la policía vasca hablar de cuotas brinda titulares

las cuotas aunque parte positivas por sí solas son insuficientes

no se aborda el necesario tránsito a una cultura organizacional que promueva la igualdad

han rechazado introducir medidas para que las mujeres no sigan siendo quienes solicitan el noventa por ciento de las excedencias para cuidado

discriminación por motivos de género en lugar de las capacidades de las personas y continuarán sin adoptar medidas para cumplir por lo menos con nuestra ley cuatro barra dos mil cinco de igualdad ez duzue berdintasun erreala eta efektiboa bilatzen

esta ley además ningunea el papel de la policía judicial y sigue dejando en manos del gobierno vasco

una carrera profesional que es discriminatoria en relación con otros organismos del gobierno vasco y que además está sujeta a disponibilidad presupuestaria

que cada año el gobierno de turno decidirá si le interesa o no invertir para que esto se cumpla

desde el punto de vista de la seguridad y la estabilidad a la que tiene derecho cualquier

este proyecto de ley introduce un par de párrafos sobre el uso de las armas

ni de proyecto de país ni de debate sobre el modelo de seguridad

ustedes creen que es una decisión tomada con altura de miras y con
altura política amaitu mesedez corresponde a las urgencias y coyunturas de otros partidos políticos por eso nos reiteramos

y no queremos formar parte ni blanquear un texto que ha sido elaborado a puerta cerrada con visión utilitarista que supone un retroceso y la consolidación de un modelo policial y de sociedad

y quería entender que era el sistema de articular de otra manera la estructura de progresar en la estructura interna de la ertzaintza de forma ordenada sin enchufismos sin clientelismo

y ahora se confirma que efectivamente es una demanda corporativa y hoy no sé si estamos en la aprobación de una ley o de un convenio colectivo un texto que efectivamente señora llanos recoge cantidades dineraria recoge

de la ley de función pública para todos los funcionarios sino que esta ley está resolviendo una situación corporativa específica de un grupo de funcionarios con respecto a otros una carrera profesional que más

o por qué ha respondido a cuánto y a cuánto no lo sabemos porque no conlleva una memoria económica más allá del

qué implicaciones presupuestarias va a tener esta ley habla de dinero sin llevar acompañada una memoria económica algo que me parece insólito ezaguna zen gure posizioa ez dut errepikatuko

ekarrita teníamos la oportunidad de haber hecho una ley que

al futuro pero se ha preferido dejar a la policía vasca en los parámetros de mil novecientos noventa y dos con un poco de cosmética poco con algún parcheo y con dinero con mucho dinero para un nuevo complemento retributivo que creo que es la única medida real que se va a aprobar hoy con esta ley una ley de artículos bises ter cuarters de técnica legislativa lamentable con incoherencias según se lea la exposición de motivos el articulado las disposiciones finales con distintas previsiones en la traducción en euskera o en la de castellano pero efectivamente con mayoría con rodillo pnv pse y pp

porque creo que este texto no puede soportar más parches más capas de remozado más maquillaje lo que queda claro es que esta reforma

una regulación perdurable en el tiempo una regulación técnicamente rigurosa de las policías vascas responde

en un más que improductivo calendario legislativo y responde al interés del pp de sacar adelante los intereses corporativos de los sindicatos instituyéndose en defensor a ultranza de la ertzaintza de esta

y el departamento también de seguridad quien le ha achacado usted ser enlace sindical de la ertzaintza pero hoy creo que le instituyen como tal

felicitaciones señora llanos porque creo que ha jugado bien sus cartas y que ha conseguido escorar el texto de esta ley

el partido popular no se ha debatido en ponencia

creo casi que en términos técnicos es la única discusión que se va a abrir la de hoy y que se va a cerrar

esta ley va a traer problemas va a traer cola con respecto a la carrera profesional explicado lo que supone pero es que además

no sé cómo se evalúa la conducta profesional el logro de resultados la implicación y compromiso con la organización cómo se evalúa con qué baremos subjetivos que apuntalan la sumisión y el servilismo de los y las agentes hacia los responsables del departamento y los jefes que van a aplicar estos baremos y que van a realizar esta evaluación los únicos criterios objetivos son los años en el cuerpo es decir se duplica el complemente de antigüedad por no mencionar alguno otro requisito sorprendente como el previsto en el artículo setenta y tres quinquis

el cumplimiento horario y la asistencia al trabajo cumplimiento horario y asistencia al trabajo como premio cierto

pero no lo regulan cómo se va a aplicar a la

trasladando el conflicto a las plantillas y a los ayuntamientos y me pregunto esta es una ley de policía o es una ley para la ertzaintza

ahora las negociaciones del complemento de carrera profesional de la policía local dónde se dirimen en los ayuntamientos

aparecerá en udalhitz se tendrá que luchar convenio a convenio con qué

ponen a los ayuntamientos sean del color que sea en un brete las concentraciones de policía que teníamos aquí delante del parlamento ahora la están trasladando a todos y cada uno de los consistorios que tienen policía local

borroka hori artikulatzeko eta konpontzeko y el tema que ayer estalló en los medios policías municipales interinos

desaparecen o no depende dónde lo leamos según la redacción del artículo veinticinco los miembros de las policías del país vasco tienen que tener condición de funcionario de carrera

no es lo mismo los interinos son funcionarios públicos pero sin plaza no son funcionarios de carrera a qué nos atenemos

pero es que noventa y cinco artículos más tarde en el ciento veinte concretamente van a aprobar hoy que cuando un ayuntamiento tenga necesidad de cubrir puestos de trabajo de forma

interinos y todos hemos leído la sentencia del tribunal supremo en casación que fija doctrina que fue promovida por un sindicato al que además yo creo que se le quería dar satisfacción con esta ley y que dicta

a derecho entonces en qué quedamos en cómo interpretamos el veinticinco en euskera o en castellano

esa era la previsión que el señor erkoreka nos decía que no les pillaba por sorpresa porque es una contradicción que ustedes hoy van a dar

atendiendo a las circunstancias necesidades identidad idiosincrasia del pueblo y veníamos denunciando señora beltrán de heredia el boicot que arkaute está practicando a las ope de los ayuntamientos bloqueando los procesos selectivos

y ahora se refuerza esta imposición no entiendo por qué un municipal de santurtzi

tendrá plaza en irun no lo entiendo si no es porque arkaute

una comisión de control y transparencia compuesta por policías para atender para controlar a policías baina denborarik ez daukadanez amaituko dut esaten

una pieza clave en la institucionalización de euskadi porque consolidaba una de las instituciones emblemáticas de nuestra capacidad de autogobierno asmatu zuen atutxa jaunak iraungo zuen legea izango zela esan zuenean ahora se propone la reforma de la ley para adaptarla a los nuevos tiempos ha habido otras cuatro modificaciones anteriores cuatro concretamente y hoy vamos a aprobar la quinta modificación de la ley de policía vasca tras dos intentos frustrados

y podemos afirmar que esta es sin duda la más importante de las modificaciones llevada a cabo hasta ahora garrantzitsua

y es necesaria para asentar las bases legales de la futura policía vasca para ello la reforma que hoy se somete a aprobación en esta cámara se centra en tres ejes

la regulación del personal de la policía del país vasco y la dotación a los municipios de herramientas para mejorar la gestión de los servicios policiales municipales respecto al primer eje los mecanismos de control y transparencia de actividad policial

el contenido del código europeo de ética de la policía se establecen mecanismos de tratamiento de quejas y recepción

y se crea la comisión de control y transparencia de la policía del país vasco organismo independiente externo a la institución policial señor martínez

multidisciplinares y cuyo nombramiento señor martínez igual la carpeta también la tenía desfasada en esta ocasión su nombramiento no se realiza a propuesta del departamento de seguridad sino del consejo de seguridad pública de euskadi estos cambios han venido fruto de la tramitación parlamentaria el segundo eje es la reforma de la regulación del estatuto del personal de la policía del país vasco ertzaintza y policía local ese que tanto le preocupa al señor arzuaga porque esta es una ley que afecta al régimen jurídico de este personal

atendiendo a la evolución de los perfiles profesionales y a la necesidad de una formación continua se amplía la edad máxima

y se obliga a que el personal participe periódicamente en actividades de reciclaje y formación permanente

para promover e impulsar la presencia de mujeres hasta alcanzar un mínimo del treinta y tres por ciento esta medida como sí puede que sea insuficiente como decía el señor martínez pero es más que cero y además está dentro de un conjunto de medidas planificadas que incorpora la ley

también se regula la carrera administrativa de los funcionarios de la policía vasca favoreciendo los ascensos por promoción interna se facilita la movilidad entre cuerpos de policía del país vasco y se regula la permuta entre funcionarios y funcionarias de policía local

y procedimientos de evaluación de dichas convocatorias y se regulan por primera vez mecanismos de carrera profesional horizontal con una implantación progresiva en los próximos cuatro años

que toma como referente lo preacordado hace siete años con la representación sindical

y ahora pasa a tenerla en lo que atañe a los derechos y deberes del personal de la policía del país vasco se contemplan diversas medidas algunas como pueden ser desaparece el deber de residencia y se contempla el resarcimiento de los daños y perjuicios de los daños padecidos durante el desempeño del servicio si el responsable de los mismos es declarado insolvente

las medidas para la protección de la salud y prevención de riesgos laborales esos de los que hablábamos de la semana pasada se da cobertura legal al servicio activo modulado por la edad

por insuficiencia psicofísica y se regula en un nuevo capítulo la prevención de riesgos laborales de un modo preciso siguiendo las pautas marcadas por la legislación vigente en la materia y que reclamaban

bezalako gaiak arautzen ditu sí se contempla la prestación de determinados servicios con armas igual que en la legislación de navarra incluso yo creo que con menos exigencias y rigor

exclusivamente a los de policía de seguridad en la vía pública y a los de seguridad y custodia y en estos el alcalde o alcaldesa con informe de la jefatura de policía local pueden decidir que se presten sin armas

o de terceras personas y esta referencia es oportuna no sé cómo el señor martínez podía haber solicitado también la paralización de esta tramitación por este tema porque hay una sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco de cinco de junio de dos mil diecinueve

a su policía como no coincidía con su planteamiento igual también era motivo para solicitar su paralización la ley contempla diversas vías

es la posibilidad de acuerdos de colaboración entre ayuntamientos para que policías locales puedan actuar temporalmente en el ámbito territorial del ayuntamiento interesado otra es el nombramiento

en municipios que cuenten con cuerpos de policía local determinadas funciones de cooperación con la policía local

habilita procesos de consolidación de empleo que posibiliten la cobertura en propiedad de las plazas vacantes el señor arzuaga hacía una lectura parcial por supuesto que el artículo veinticinco reconoce y ese era el objetivo que son funcionarios de carrera pero ha leído parte del artículo ciento veinte hay que leerlo todo

titulada procesos selectivos de consolidación de empleo en los cuerpos de la policía local esta cuestión no es de ayer que salió en prensa sino que ya lleva desde por lo menos dos mil dieciséis sobre la mesa y ha sido objeto también en las comparecencias y en las enmiendas

medidas para permitir a los ayuntamientos afrontar las consecuencias que tal doctrina pudiera tener por lo tanto en vez de paralizar creemos que es motivo para aprobar la ley con más interés

encuentren ante una situación de inseguridad y tampoco los funcionarios afectados se regula también la figura del agente de movilidad en municipios de gran población para regular el tráfico urbano como colaboradores de la policía local

equiparándola a todos los efectos a la de los agentes de escala básica de la policía local

porque como ven no es una única medida son muchas medidas y hay muchas más muchas más que son medidas

y reuniones llevadas a cabo durante los últimos meses escucha activa diálogo y sobre todo voluntad de acuerdo señor martínez por lo tanto se trata de una modificación importante y una demostración de que a través del acuerdo y el diálogo se puede avanzar en este país y queremos agradecer todas estas aportaciones

y la predisposición del grupo popular al diálogo y al acuerdo lo cual es básico para sacar adelante

el mismo partido popular al que ustedes intentaron convencer para que devolviese el proyecto el informe de la ponencia incorpora a las enmiendas presentadas por los dos grupos que sustentan al gobierno y la mayor parte de las defendidas por el grupo popular en concreto de las cincuenta y siete presentadas

erabat kontrakoa nahi dute el dictamen aprobado en comisión el pasado doce de junio es fruto del trabajo del debate y del acuerdo entre grupos parlamentarios que han sido capaces de dialogar constructivamente

y consecuencia de ello han sido numerosas las aportaciones y modificaciones introducidas durante esta fase de tramitación parlamentaria hablaban de tramitaciones exprés saben qué día aprobó el gobierno este proyecto de ley el veintiséis de junio de dos mil dieciocho saben qué día es hoy

y el debate de las enmiendas a la totalidad y el examen de las enmiendas parciales presentadas confirmaron por parte de elkarrekin podemos y euskal herria bildu una falta absoluta

de abstracto de la seguridad humana que parecía que habían inventado antes de ayer para oponerse frontalmente a la tramitación del proyecto de ley incluso como decía buscando

después presentó muchas enmiendas efectivamente ciento cuatro pero no se trata de una cuestión de cantidad

sino de calidad y sobre todo de voluntad de querer aportar algo en positivo

o con pequeños retoques formales pero elkarrekin podemos las ha rechazado coherencia ha rechazado también las que iban a ser aceptadas y que sinceramente hubieran podido mejorar la ley y también ha rechazado nuestra propuesta de transacción a veinte de sus enmiendas donde se aceptaban sustancialmente sus propuestas en asuntos a los que luego

o la integración con la ciudadanía diálogo con voluntad de acuerdo

o rechazan las mismas en fin que es digno de hacérselo mirar termino señora presidenta

tenemos que presentar una enmienda de totalidad con petición de devolución del proyecto pues no es la mejor manera de posicionarse para negociar cuando alguien quiere acordar pues muestra disposición al acuerdo y no ha sido su caso nos daba lecciones el señor

hay elementos de comparación dice que no le gusta la comisión de control y trasparencia tampoco creo que ha visto la última redacción porque prefieren

y que son funciones que actualmente ya tienen un responsable el defensor del pueblo y que tiene un ámbito de actuación diferente y más amplio que el policial

aunque tenga como decía muchos puntos en común con la ley de policía navarra que el año pasado promovieron y apoyaron

ni la regulación de las armas de las policías locales como le decía es más el candidato tiene que presentar un escrito que se compromete a aportar armas y solo en el caso es a sensu contrario en el caso de que haya circunstancias que se justifiquen motivadamente se le podrá eximir de llevar el arma

de una ley que establece una pasarela para el acceso a la guardia civil y la policía nacional a policía foral aquí ven con recelo los avances en los derechos de los trabajadores de los cuerpos policiales

en fin es muy difícil extender consensos con planteamientos destinados desde el principio y hasta el final hasta hoy a la mañana

que como decía el señor atutxa esperemos que tenga mucha vigencia y que sirva para el futuro de la policía vasca y para regular a los más de diez mil personas que integran las plantillas de dicha policía vasca y lo hagan con dignidad

buenos días de nuevo a todos yo voy a empezar también dando las gracias a los grupos que apoyan al gobierno

poder acordar esta ley que aunque es verdad que han sido muchas conversaciones y muchas

creo que la voluntad de acuerdo estaba en los tres grupos y por ello ha sido posible sacar la ley simplemente con relación a las dos enmiendas que nosotros mantenemos nosotros también estamos de acuerdo con una policía bilingüe la propia policía está de acuerdo con una policía bilingüe

en que en este momento las condiciones precisamente para alcanzar ese bilingüismo para euskaldunizarse no son las mismas que en el resto de los funcionarios públicos de euskadi por lo tanto hasta que esas condiciones no sean las mismas pues nosotros consideramos que no se les puede

con relación a elkarrekin podemos la verdad es que qué suerte ha tenido usted de la sentencia porque si no llega el tribunal supremo a sacar esa sentencia no sé qué hubiera contado usted hoy aquí porque se ha quedado sin discurso

todas sus enmiendas con lo cual estará de acuerdo con la ley cuando uno retira las enmiendas y no las mantiene es porque está de acuerdo

habla de rodillo mire como le digo nosotros hemos igual que usted ha hablado con todos o ustedes han hablado con todos los sindicatos con todos los afectados nosotros también

si cuando hemos intentado acordar algunas enmiendas con ustedes y transarlas las han retirado para que no haya posibilidad de transacción tienen ustedes un concepto del rodillo

incluso ha retirado cuestiones que se iban a transar relativas precisamente

a lo relativo a las cuotas como usted decía a la incorporación de más mujeres en la ertzaintza que efectivamente no es cuestión de cuotas

de hacer atractivo a las mujeres la ertzaintza y en este momento creo que no lo es y eso va mucho más allá del establecimiento de cuotas pero ni tan siquiera han querido ustedes mantener y con relación ya en la enmienda de totalidad es que ustedes hablaban como se le ha dicho aquí

como si fuera la compilación el código de eurico todo lo relativo a la seguridad para no entrar verdaderamente a acordar

a bildu yo lo que no sé es por qué si otros trabajadores hacen reivindicaciones

y sin embargo cuando las hacen los policías se les criminaliza por ello es que no lo entiendo y son corporativistas con relación a las protestas hasta mayo

cuando hay altercados pero hasta mayo estaba realizando protestas en las comisarías por ejemplo en mayo estuvieron en la comisaría de durango

tienen como finalidad su sueldo como usted ha dicho

que tienen que lo que responde es a un pensamiento una obsesión

ven una policía siempre bajo sospecha una policía

una policía que coarta los derechos de los ciudadanos ustedes tienen una desconfianza congénita una animadversión estructural hacia la ertzaintza y hacia la policía vasca y una animadversión exclusivamente por hacer su trabajo

que han tenido que tomar medidas de autoprotección todos los días que no podían revelar la profesión a la que se dedicaban a pesar de estar súper orgullosos de ella porque si no podían ser apaleados

cómo les perseguían a ellos a sus familias cómo les han insultado llamándoles cipayos han vivido todo ello

a hablar de modelos policiales hayan condenado ni uno de esos ataques fascistas y mafiosos de quienes quieren una policía sin armas pero que sin embargo

que hubiera quienes llevasen armas o bombas para atacar a esos policías o a todos aquellos

la libertad la democracia y la pluralidad usted me dice que yo soy defensora de la ertzaintza

de esta policía la local y del cuerpo de alguaciles y muy orgullosa de ser

porque desde nuestro grupo precisamente por ese trabajo que realizan por la defensa de los derechos y

tenemos una confianza absoluta en ellos porque como dije aquí cuando se debatieron las enmiendas a la totalidad la seguridad en abstracto no existe la seguridad la dan todos los días hombres y mujeres que salen a la calle

nuestros derechos y libertades por ello estamos muy satisfechos de haber podido contribuir mediante la aprobación de esta ley a que puedan desarrollar mejor y más eficazmente su trabajo por ello acabo mi intervención con el reconocimiento las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pero especialmente y aquí a nuestra policía vasca a nuestro cuerpo de alguaciles a nuestra policía local

gracias a ellos muchos hemos podido dedicarnos a ser la voz de muchos vascos y de muchas vascas en esta cámara y en otras instituciones por ello
tienen nuestro eterno reconocimiento y nuestro eterno agradecimiento muchas gracias eskerrik asko llanos anderea

presidenta señorías señor arzuaga ha utilizado usted y muy mal

el refugio en el que se ha querido meter para oponerse a esta ley nos ha dado aquí una larga intervención de técnica jurídica de técnica traductora incluso para

se ha permitido el lujo de acusar a los sindicatos de corporativistas y de dejar a un lado la seguridad para importarles exclusivamente

y todo un despropósito conociendo su trayectoria una trayectoria que

por las siguientes cosas la primera por

porque nunca ha cedido a considerar héroes a los delincuentes a los terroristas

y efectivamente esto ya ha provocado una sentencia y una animadversión permanente sobre la policía muchos han sido sus episodios en esta cámara diciendo

muchos efectivos que le sobran efectivos incluso ha llegado a decir

como que si en esta sociedad hay pocos médicos o pocas enfermeras o pocos profesores es porque hay muchas policías

todas las actuaciones de la policía las ha puesto bajo sospecha

la señora llanos jamás ha tenido una actitud hacia un servicio público como es el de la seguridad y esto es lo que define su planteamiento de oposición política

a esta ley y además bueno en las últimas actuaciones poco más o menos nos ha venido a plantear que el futuro de la policía es más o menos

policía más bien de entretenimiento que una policía de seguridad y una policía de acción o una policía integral bueno tenga el valor de defender

rotundas y contundentes que lo viene haciendo en otras ocasiones y no refugiándose en la técnica de traducción la técnica jurídica o en el supuesto corporativismo de los sindicatos en relación al señor martínez también se lo ha dicho la señora llanos que bien le ha venido la sentencia del tribunal supremo para hacer la intervención hoy aquí pero que mal le ha venido para saber interpretar la política porque

me ha dado la impresión de que usted estaba flotando sobre la propia sentencia del tribunal supremo mire por si todavía no lo sabe yo se lo digo usted pertenece al poder político pertenece al poder legislativo el tribunal supremo que pertenece al poder judicial lo que hace

por lo tanto no tenga ninguna duda de que esta ley la que se va a aprobar hoy si no le va a servir al tribunal supremo para haber resuelto la sentencia

así lo quieran al tribunal constitucional para saber que es una ley que tendrá que ser considerada para cualquier recurso que se pueda plantear en fin me extraña mucho este planteamiento ustedes que nacieron para desafiar las leyes ustedes que nacieron para poner en cuestión todo el sistema

en una sentencia para hacer un discurso político y para tratar de enmascarar ese proyecto de seguridad que dicen tener que como les he dicho en mi anterior intervención es tan idílico que es inexistente y nadie sabe dónde se ha podido poner en práctica

les pediría que fueran más valientes y más atrevidos con la política

menos detrás de sentencias que a fecha de hoy todavía a pesar de haberla leído

bueno yo sé que algunos de los parlamentarios que sostienen al gobierno y al igual que en el debate de la enmienda a la totalidad están más ocupados en desacreditarnos ningunear nuestro trabajo

más que articular argumentos solventes y responder con soluciones concretas yo no voy a entra mucho a eso porque

o incluso incapacidad para responder con una serie de argumentos políticos a propuestas políticas sí que voy a hacer un par de anotaciones le voy a decir al señor zorrilla que se entere un poco mejor de cómo fue la previa a la ponencia porque creo que estaba usted un poco equivocado y sino pregúntele a la señora nerea llanos o igual nerea llanos no sé qué película le ha contado y por otro lado le diría a la

que hay que estar más atento cuando intervienen los demás porque parece que ustedes que no han escuchado dos tercios del discurso que yo he hecho pero como veo que no lo han escuchado yo se lo repito no se preocupen y les cuento cuáles son aquellas

a las que hemos atendido y que no entendemos que no estén presentes en una ley como esta así que voy a empezar

la comisión de control y transparencia empezando primero por citar una serie de cuestiones que creo

cito los problemas más frecuentes continúan siendo la demora en proporcionar la información la falta de respuesta

por las que el ararteko se interesa y a las recomendaciones que formula y no remitir la documentación solicitada esto es lo que se afirma en el último informe anual del ararteko en relación con el departamento de seguridad y el área de seguridad

que representa a toda la ciudadanía vasca pero es que además el informe señala que continúan sin establecerse un número más que significativo de las recomendaciones

han pasado ocho años y se siguen detectando incumplimientos etcétera

ya tenían uno nosotros les proponemos que toda esa estructura esté bajo el ararteko y lo que hacemos es proponer un órgano de control que efectivamente norma el consejo de seguridad pública con mayoría gubernamental o sea que en fin nos quedamos igual en cuanto a la igualdad

que con las cuotas se van a resolver la desigualdad en la policía vasca hace cuarenta años

es imposible que todos sabemos que las cuotas de por sí solas

elkarrekin podemos propuso medidas concretas para avanzar en el acceso y en la carrea profesional de las mujeres para eliminar la segregación horizontal y vertical motivado por prejuicios y estereotipos de género

para implantar medidas de corresponsabilidad para implantar medidas de acción positiva

una institución libre de discriminación directa o indirecta libre de violencias machistas y libre

han rechazado todas las enmiendas que proponen esto todas y

una de ellas que era la que tenía un mínimo de contenido era para aceptar

eso es lo que nos han propuesto eso es lo que nos han propuesto y si quiere

saco al público la propuesta de transacciones que nos han hecho ustedes y me dice usted cuántos temas troncales y fundamentales de la ley se tratan en esa propuesta de transacciones que es bastante vergonzosa pero es que encima ustedes han rechazado enmiendas

han rechazado enmiendas para avanzar en una policía de cercanía en una policía preventiva y no reactiva en una policía que apuesta por el diálogo para solucionar los conflictos en una policía que protege el bien común los derechos ambientales que actúa incorporando la perspectiva de género que protege a las personas y sus derechos como el derecho a huelga

porque todavía arrastramos un modelo policial reactivo y podría aquí empezar a hablar sobre una serie de intervenciones que creo que han sido negativas

para otro momento voy a finalizar muy claramente

policía vasca cercana para una sociedad del siglo veintiuno y lo que hoy se ha demostrado aquí sobre todo

es que les molesta les molesta que se planteen modelos alternativos de seguridad

y eso eso ha cambiado y eso ha terminado porque

vamos a traer propuestas alternativas en materia de policía propuestas alternativas en materia de seguridad

modelos de libertades y derechos humanos apostaremos por una policía transparente que actúa siempre dentro de la legalidad y los derechos humanos que prioriza la prevención la protección de las personas y la persecución de delitos que atentan contra el bien común las libertades la justicia social la igualdad la sostenibilidad ambiental y de la vida una policía vasca integrada por mujeres y hombres en igualdad con condiciones laborales dignas con la formación los recursos

con garantías para los propios agentes y por supuesto para la ciudadanía en su conjunto esto es una policía al servicio de la ciudadanía vasca eskerrik asko

presidenta señorías si les digo que el señor prieto no se ha leído la ley desconoce la propuesta de reforma que nos traen no se ha mirado el acuerdo que nos ha traído el pnv psoe pp se lo creen

delante de los ojos derrochando arrogancia haciendo un discurso tan superficial como vacuo como frívolo y me reprocha que le

técnica legislativa cuando estamos hablando de una ley qué quería venir aquí a ofrecer los tres titulares vacíos que usted

sobre las consecuencias y sobre los efectos que va a tener esta ley sobre los problemas las implicaciones prácticas que va a traer esta chapuza legislativa

a arzuaga no le gusta la poli tengo animadversión hacía la policía no

este modelo policial no me gusta el modelo policial que se asienta con esta reforma legislativa y de algo si me alegro de que no haya habido debate

y me libera de tener un debate de titulares con quien cree saber algo y lo ignora todo

quiere decir que la policía española tortura efectivamente

tiene una influencia importantísima en el proyecto de ley que hoy se está aprobando una gran ascendencia sobre lo ha conseguido yo creo que ha movido bien sus cartas ha utilizado bien sus y ha conseguido desequilibrar la balanza del modelo policial de la ertzaintza a su modelo

se escora hacía el modelo de seguridad que propone el pp y este modelo de la ertzaintza va a acoger la reivindicaciones que ha traído el pp

produktua y con entorno a los municipales interinos sabían por providencia del treinta de abril de la sala cuarta

intuían la decisión y si no la intuían podían haber esperado porque el veintiocho de marzo nos traen el texto de rodillo que se le ha llamado tuvieron tiempo para que no les coja por sorpresa como decía erkoreka prevenían una eventualidad de este tipo y adoptaron medidas cuál el artículo ciento veinte que contradice esta sentencia que choca frontalmente con lo que está diciendo sentencia y nos dicen que ahora van a salir doscientos setenta y siete nuevos udaltzainas de la

y yo pensaba que era para completar las plantillas maltrechas por el caos por la falta de previsión por jubilaciones o por el boicot que está haciendo arkaute para que se

y ahora parece que con estos doscientos setenta y seis nuevos udaltzainas van a rellenar seiscientos once puestos ocupados por eventuales porque no me dan las matemáticas

profesionales porque para ellos ustedes no han tenido en cuenta ningún proceso de integración ninguna transición ningún tipo de puente para convertirlos en policías de pleno derecho o para convertirlos en auxiliares y la pregunta que hago es ahora

degradarlos precarizarlos a la calle con ellos amaitzen dut eta podemosekin yo creo que ustedes ahora tenían que solicitar un receso debían posponer esta votación aplazar la toma de consideración de esta ley que es una chapuza o si no aprobarla y atenerse a las consecuencias porque nos va a dar mucho que hablar argi nuen zer ez zen konponduko lege honekin hau da ereduaren kontua

eskerrik asko legebiltzar buru andrea mire señora llanos el tema del euskera está partido nacionalista vasco y lo que usted plantea solo se sirva como criterio de desempate lo que implicaría que el conocimiento del euskera valdría menos

es consciente la gente que se está presentando de la importancia y la necesidad del conocimiento y la utilización de nuestra lengua señor martínez

le ha venido muy bien la cortina de humo de la sentencia que salió en los medios de comunicación ayer

de qué nos iba a venir a hablar del modelo de seguridad humana yo creo que le ha venido muy bien

nos hablaba otra vez de la tramitación exprés que usted nos diga algo de la tramitación exprés cuando ya le he dicho que la tramitación ha sido un año y un día

sobre el cumplimiento del calendario legislativo pues tiene también cierta cuestión

que empiece el gobierno a negociar en serio y con el objetivo de llegar a acuerdos

eso es lo que hemos hecho nosotros y eso es lo que usted no puede decir que han hecho con esta ley dice que se trata de responder

también incluso para los funcionarios interinos hablaba de que hay que estar más atento yo también lo digo que hay que estar más atento porque volvía a incidir sobre la comisión de control y transparencia

el último informe del ararteko pues precisamente son las propuestas que hizo el ararteko en la comisión parlamentaria las que se han recogido sobre esta materia de la comisión de control y transparencia hombre y que diga que no es a propuesta del departamento de seguridad como ha dicho en su primera intervención sino que esa propuesta el consejo de seguridad pública de euskadi

sabe usted quienes forman el consejo de seguridad pública de euskadi todos los niveles

diputaciones y ayuntamientos de las capitales quizás es que la sociedad vasca en este caso ha querido que sea el mismo partido que lidere esas instituciones ustedes que son tan demócratas no creo que pongan en duda esa representatividad

forma parte de ella también representantes del poder judicial y de la fiscalía el consejo vasco de la abogacía etcétera etcétera yo no creo que estos sean miembros gubernamentales hablaba de las medidas de igualdad que hemos rechazado todas que una pequeña modificación de lenguaje entre las nueve bueno pues si es una es una le vuelvo a decir ustedes

ninguna propuesta más ninguna propuesta más ninguna propuesta es igual a nada

y le repito en la ley a parte de esa medida hay un conjunto de medidas para intentar que puede haber más veinte propuestas de transacción se le hicieron y ninguna aceptaron ninguna ninguna

y temas troncales hombre que son temas troncales los temas troncales no hemos tratado aquí porque eso ya los trató en la enmienda de devolución respecto a eh bildu

rodillo como usted denomina le presentaron en comisión el proyecto de hecho el pleno de devolución fue el once de abril el once de abril le ha fallado el mes fue veintiocho de mayo fue veintiocho de mayo

para nosotros sí también lo es junto con la protección social la educación la sanidad el empleo también la seguridad pública es una prioridad

el movimiento se demuestra andando y ustedes llevan andando bastante trecho el problema suyo

es que a pesar de que la ertzaintza es de todos y todas que le quede claro no le gusta la ertzaintza

y como digo lo han demostrado durante años con palabras con hechos y con silencios y ausencias

con palabras cuestionando el número de efectivos cuestionando los dispositivos policiales con intención de desacreditar

esta misma semana en una comparecencia usted reconocía que teniendo pocos datos y poca información

el dispositivo policial con hechos intentar paralizar las ope

incluso reducciones de sueldo aquí se ha dicho ustedes son los defensores de los trabajadores será de otros trabajadores qué pasa que los que forman parte de la ertzaintza son trabajadores distintos la academia esa academia

planteaban reducirla un cuarenta por ciento cuando nosotros creemos que la academia es fundamental en la formación y preparación de un nuevo modelo policial y de nuevos agentes y finalmente los silencios y ausencias el pasado dos de junio hubo un homenaje a quince ertzainas asesinados por eta en arkaute con un del museo hemen gaude donde estuvimos representantes de todos los grupos políticos

ausencia muy significativa para todos y todas los allí presentes dice que no le gusta el modelo

nosotros queremos una policía formada preparada moderna y adecuadamente equipada asumiendo el compromiso con la seguridad de las personas y de los bienes personales y colectivos

no sabemos cuál es su modelo si es el modelo escocés desarmado actualmente cuestionado si el modelo navarro armado si es el modelo de la policía local

que diga que se ha cercenado el debate nunca se ha cercenado el debate en este parlamento desde mil novecientos noventa y dos que se aprobó la ley de policía vasca ustedes

ninguno sobre el modelo policial lógicamente no es una cosa que les preocupa ahora sí el último recientemente le puedo decir sobre política penitenciaria

no está transferida ahí está su interés y tampoco ha habido ninguna proposición de ley al respecto

y policía local con la aprobación de esta ley creo que es motivo de felicitarnos todos y todas y felicitar también a la señora consejera

por los magníficos profesionales de los que está rodeado creo que merece la pena también hacer un reconocimiento porque no todo van a ser críticas y creo que estar rodeado de unos magníficos profesionales que han hecho posible

que los grupos parlamentarios que los agentes sociales pudieran llevar a cabo y sacar adelante esta ley

laurogeita seiko estatistika legearen ostetik solamente les diré que pienso que la estadística oficial

bajo consideraciones estrictamente profesionales y que genera un sistema estadístico coherente y eficaz es un elemento indispensable en la conformación del sistema de información de las sociedades democráticas tener información estadística básica fiable

resulta imprescindible e irrenunciable desde el punto de vista institucional para proyectar políticas públicas racionales y para el fin de transparencia política

de estadística dos mil diecinueve dos mil veintidós que hoy les presento

durante dicho periodo de vigencia ha de ser objeto de aprobación mediante ley y se ejecuta y desarrolla a través de los programas estadísticos anuales que son aprobados según establece el artículo siete de la ley

por decreto del gobierno vasco nada de ello les será ajeno probablemente tampoco han variado mucho las directrices que a lo largo de los anteriores planes han servido para su elaboración

con la mirada puesta en la cobertura de las siguientes finalidades en primer lugar generar información estadística para diseñar y evaluar los planes

de la organización estadística vasca para disminuir la carga a los informantes utilizando datos administrativos como fuente

para asegurar la calidad de las estadísticas garantizando el cumplimiento del código de buenas prácticas de las estadísticas europeas y también para adaptar los productos y servicios a las necesidades de las personas usuarias el gobierno vasco y este parlamento han sido conscientes de la necesidad de disponer

y coherentemente han promovido desde tiempo atrás la creación de una estructura estadística básica aprobando leyes y presupuestos para su impulso prueba de ello son cada uno de los siete planes de estadística aprobados hasta la fecha

de la ley de estadística configurando una organización estadística donde las funciones de planificación y normalización residen en el euskal estatistika erakundea instituto vasco de estadística eustat

además de en eustat están distribuidas entre los órganos estadísticos específicos de los departamentos del gobierno

la comisión vasca de estadística y el consejo vasco de estadística como órganos consultivos

además adaptar la actividad de la organización estadística vasca a las nuevas necesidades de información estadística y asimismo acomodar

de protección de datos de las personas físicas y a la utilización de los datos administrativos como fuente de información estadística para disminuir la carga

el conjunto de las estadísticas que se elaborarán hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veintidós establece qué información se ofrecerá

las estadísticas y quién se encargará de su elaboración de este modo tanto los productores de estadísticas como las personas usuarias de las mismas podrán conocer cuál será la producción y por tanto la disponibilidad de la información estadística de la comunidad autónoma de euskadi hasta el año dos mil veintidós

es fruto de la reflexión de los distintos agentes sociales reunidos

gobierno vasco diputaciones forales parlamento vasco juntas generales ayuntamientos universidades asociaciones empresariales sindicatos

y asociaciones de consumidores correspondiendo al gobierno vasco trasladar a este parlamento para su aprobación las necesidades de información que se han planteado

se modifican cuatro artículos de la ley de estadística para adaptarla a la nueva normativa europea de protección

del código de buenas prácticas de las estadísticas europeas en el uso de la información administrativa como fuente de operaciones estadísticas y a las tecnologías de la información y comunicación en el anexo

para cada una de ellas las siguientes características objetivos generales

organismos participantes área temática situación periodicidad de la difusión y clase de operación

contempla la realización de doscientos veintinueve operaciones estadísticas ocho menos

y treinta y uno bajas cuantitativamente el eustat es el responsable de ciento veinticuatro operaciones estadísticas el cincuenta y cuatro coma uno por ciento del total de operaciones aunque suponga el setenta y tres coma dos del coste total

tienen la siguiente distribución medio ambiente planificación territorial y vivienda veintiuno operaciones

veintiuno operaciones cultura y política lingüística quince empleo y políticas sociales doce salud doce operaciones también

cuatro operaciones al igual que seguridad también cuatro operaciones y también igual que trabajo y justicia cuatro operaciones y turismo comercio y consumo

se agrupan en veintidós áreas temáticas la de mayor coste es la de infraestructura estadística

que asumen el trece coma treinta y ocho por ciento del coste total demografía y hábitos sociales agrupa

y en tercer lugar las cuentas económicas con veintiséis operaciones y un coste del diez coma setenta y dos del coste total por otro lado

incluidas en este plan también podemos diferenciarlas

por la periodicidad de difusión de los resultados ya sea quinquenal veintitrés operaciones bienal veintidós operaciones anual noventa y tres

veinticuatro operaciones además de otras veintisiete operaciones estadísticas

previstas de difusión siendo también las formas de difusión mayoritarias a través

a través del banco de datos y también por la clase de operación estadística ya sean censales de las que hay sesenta operaciones

cincuenta y cinco operaciones o seguidas de operaciones de síntesis que son cuarenta y seis operaciones

agradecer a los miembros de la comisión de hacienda y presupuestos y en general a todos los miembros de esta cámara su buena disposición

la aprobación de la presente ley y en definitiva la aprobación de la planificación de nuestra actividad estadística durante estos próximos cuatro años eskerrik asko guztioi

por el hecho de que una de nuestras enmiendas sí haya sido tenida en cuenta y nos parece que es una enmienda importante es una enmienda que afecta

de la cuestión de la perspectiva de género y la aplicación de la ley de igualdad de hombres y mujeres es cuestión la perspectiva de género no se tenga en cuenta solamente a la hora de diseñar las estadísticas sino también en la explotación y en el análisis de los datos necesitamos unas buenas estadísticas para poder diseñar unas buenas políticas que contribuyan a mejorar a buscar la equiparación la igualdad entre mujeres y hombres y por lo tanto nos felicitamos de que esa enmienda en concreto sí haya sido aceptada por el gobierno como no podría ser de otra manera porque estaba una recomendación de emakunde y aquí sí me parece

en la tramitación de las leyes como una entidad florero porque tenemos más leyes encima de la mesa y llegará la ley de cooperativas donde el legislador

no ha hecho ningún caso a las recomendaciones de emakunde durante la preparación del anteproyecto de ley en este caso se ha subsanado

y mi tercera reflexión será para defender la enmienda que ha traído nuestro grupo a pleno en el día de hoy

obligados a suministrar la información estadística que serán todos aquellos que tengan la residencia el domicilio o que estén ubicados en el territorio de la comunidad autónoma del país vasco este artículo diez ha sido modificado

por una disposición adicional primera que mantiene esa redacción pero introduce un punto cuarto que a nuestro juicio quizás por una reacción desafortunada

que la información los ficheros

serán todos estén donde estén se encuentren donde se encuentren y sea cual sea la administración que los posea

de alguna manera puede introducir un factor de inestabilidad un factor de discordia entre las diferentes administraciones que tienen responsabilidades

que en nuestra comunidad autónoma a través del punto treinta y siete del artículo diez del estatuto de autonomía tiene competencia exclusiva en materia de las estadísticas que le competan para sus fines

para todo el territorio que no sea la comunidad autónoma del país vasco y por lo tanto hubiera sido interesante desde nuestro punto de vista acudir a lo que marca el código de buenas prácticas en materia de estadística a nivel europeo que dice que hay que potenciar

y la cooperación entre las diferentes administraciones para que aquellas personas administradas que tengan que suministrar la información no tengan que hacer un trabajo doble o triple

porque existe una ley la ley de dos mil quince que habla del régimen jurídico del sector público donde se establece en el apartado

de prestar la cooperación necesaria al resto de administraciones para que puedan cumplir sus objetivos

meter esta premisa meter esta consideración para evitar problemas futuros

esta consideración esta enmienda porque nos resulta importante interesante que la actuación de las administraciones y voy terminando señora presidenta en materia estadística sea la de cooperar y no sea la de

dos ejemplos en este caso el producto interior bruto de euskadi a día de hoy a finales de dos mil dieciocho es de setenta y seis mil seiscientos millónes de euros si miramos la estadística del eustat y de setenta y cuatro mil millónes de euros si miramos la estadística del ine hay más de un tres coma cinco por ciento de diferencia en el pib el pib señoras y señores se utiliza para calcular el cupo vasco

y lo mismo podríamos decir del producto interior bruto en materia industrial

en un veintiuno coma seis por ciento y el ine en un dieciocho coma ocho por ciento entonces no es una enmienda baladí la que traemos a día de hoy aquí

y no es una cuestión menor el que el administrado la administrada las consultoras las empresas el sector económico de este país tenga unas estadísticas que sean elaboradas con la cooperación de las diferentes instituciones de las diferentes administraciones y no desde que cada uno haga la guerra

eta udaletxeak además en el consejo vasco de estadística también están representados además de estas administraciones públicas este parlamento las juntas

asociaciones de consumidores y profesionales en la materia

esta cámara aprobó la primera ley vasca de estadística que fue

y de esta ley derivan los planes como el que hoy tenemos que aprobar en esta cámara con rango de ley el consejo vasco de estadística aprobó ya hace prácticamente año y medio en febrero

y la comisión de hacienda de presupuestos hizo lo mismo con el dictamen hace quince días

para este pleno enmienda a la que nosotros votaremos en contra por dos motivos ya lo ha dicho el señor becerra el artículo diez punto treinta y siete del estatuto de gernika prevé que la comunidad autónoma de euskadi tiene competencia exclusiva

pero por otra parte hay una ley estatal que es la ley de función pública que obliga a las administraciones a colaborar y por lo tanto la preocupación que usted tenía primero nunca

y no vemos peligro en que esto no ocurra hainbat emendakin aurkeztu dira batzordean eta

muchas gracias señora presidenta isiltasuna mesedez lehendakari consejeros señorías buenos días

parlamentario popular ha votado a favor de la tramitación de esta ley su aprobación definitiva porque todas las

que presentamos al proyecto que había traído aquí el gobierno fueron aceptadas por los grupos que sustentan al gobierno señor lehendakari no vamos a decir que este es precisamente

las condiciones de diálogo y de colaboración entre los grupos son buenas

haber jugado al me enfado y no respiro pero creemos que es necesaria una cierta madurez política en esta cámara y cuando las cosas no salen como a uno no le gustan

salvo que el verdadero contenido es que uno no tiene nada que decir ni nada que aportar para mejorar la norma y en ese caso se quiere quedar directamente fuera de juego

la labor de los portavoces con los que hemos llegado a ese acuerdo tanto el partido nacionalista vasco como en el trabajo aunque no haya habido un acuerdo definitivo con el de elkarrekin podemos

celebramos todos juntos que esta ley esté en marcha

un camino abierto para que otras también puedan salir adelante después

octavo plan como bien se ha dicho al que también el grupo socialista ha dado el respaldo

constituye un elemento ordenador de la actividad estadística que se tiene que desarrollar en los próximos cuatro años en esta comunidad autónoma mi grupo ha dado el respaldo a esta ley que da continuidad a los planes anteriores en materia estadística y de la que ya apostó

y es probable que esta ley en un pleno tan cargado de asuntos como el de hoy algunos con una cierta intensidad mediática

la ley que hoy hemos aprobado para los ciudadanos y las ciudadanas para las instituciones públicas y para todos los que estamos implicados en la organización

porque desde el grupo socialista defendemos la importancia de un sistema de estadísticas fiables porque gracias a la información estadística

podemos tener un conocimiento de la realidad en la que nos encontramos y ese conocimiento es el que nos permite planificar la acción política y tomar decisiones que sí son

y hacia dónde vamos conocer la situación concreta de una forma rigurosa para poder desarrollar políticas públicas acertadas también como se ha pedido desde el grupo de elkarrekin podemos para el logro efectivo de la igualdad

y mujeres por eso el tema de la aceptación de la enmienda relativa a la incorporación el tema de las perspectiva de género

lógicamente tener una información de calidad una información objetivo una información suficiente una información útil para entender y encauzar los problemas a los que nos debemos enfrentar y a los que los

son datos que deben ser recogidos bajo criterios de independencia de transparencia tienen que ser datos inteligibles accesibles y fundamentalmente reutilizables

ya ven yo creo que hay argumentos más que suficientes para considerar que es una ley necesaria y sobre todo muy útil para la ciudadanía yo finalizo mi intervención como han hecho otros

y el alto consenso alcanzado entre quienes de forma responsable hemos decidido trabajar en el trámite de esta ley para el bien de los ciudadanos y ciudadanas a los que décimos representar nosotros no nos hemos dejado llevar tampoco por rabietas infantiles sin más

gracias presidenta y buenos días a todos cuando este parlamento en su día llevó a cabo el debate de en aquel momento proyecto de ley de no discriminación por motivos de identidad

se pretendía dar respuesta facilidades y soluciones concretas

fue una ley que en su día entendíamos pionera se pretendía un texto ambicioso y el debate en ponencia resulto enriquecedor pretendió dar soluciones y facilitar algo tan esencial como el respecto a la identidad de cada uno y de cada

aquel día comenzamos aún hoy la identidad de género no ha sido despatologizada por parte de la oms nos causa dolor y sorpresa que estando modificando

en cuanto a identidad de género fundamentalmente en los y las menores nos encontramos con una organización mundial de la salud que habla de incongruencia de género manteniendo

dentro de la diversidad sexual que más violaciones de derechos humanos sufren

porque su identidad es negada en algunos estados cuando en otros les fuerzan a someterse a tratamientos o requisitos que entendemos inaceptables por eso me resulta hoy difícil y emotivo encontrar las palabras más adecuadas para explicar el voto favorable del grupo socialista

como es la eliminación del requisito de un informe psiquiátrico previo al resto del proceso todavía la sociedad tiene etapas que recorrer

nos enriquece como sociedad pero sigue habiendo personas que siguen sin atreverse a definir su identidad por miedo al rechazo esto sucede especialmente en los niños niñas y adolescentes hay muchas personas transexuales que aun esconden su verdad

por eso no se puede negar el sufrimiento ni las consecuencias a veces irremediables de los niños y las niñas que forman parte de este colectivo

incluye una amplia realidad y muchos matices que van más allá de una mera cuestión de cromosomas y genitales

de historias sórdidas y marginales que deshumanizan a estas personas por salirse de las expectativas pero la visibilidad que en los últimos tiempos se ha dado en la infancia y la adolescencia transexual nos ha conducido a una especie de pacto social de reconocimiento de estos menores y adolescentes

el hecho de que es una realidad a respetar a reconocer y a proteger por eso es muy importante que nuestra actitud sea la actitud de estos padres y madres que hoy nos acompañan y que han impulsado esta modificación de ley la de escucha y respeto ante estos menores

no hay nada que el o la menor tenga que integrar quienes deberán ajustar sus expectativas somos el resto de componentes de la sociedad lo cual como estamos viendo en muchas ocasiones

es lo más complicado para ellos conseguir el bienestar

es responsabilidad no solo de sus familias y de su entorno sino es responsabilidad de la sociedad y sobre todo que es quien tiene que poner en marcha las herramientas necesarias para ello la infancia y la adolescencia es un momento vital en el que se producen muchos cambios físicos emocionales y psicológicos orientados a que cada persona encuentre su propia identidad si un adolescente o un menor transexual no encuentra el apoyo de su entorno de su familia

y su identidad sexual puede verse atrapado en una situación absolutamente dolorosa

que de la mano de sus hijos realizan el trayecto más importante de sus vidas aceptar

quiero que sepáis que además de hacer más fácil ese recorrido les evitáis años de dolor

y aceleráis el logro de esa felicidad que es el objetivo de cualquier madre y padre

que en nuestra opinión por tanto todo mi reconocimiento y el de mi partido político

en entredicho en los tiempos que corren sigo creyendo que la política sirve para algo

antes de terminar quisiera hacer un reconocimiento especial

a pesar de vivir con la ausencia de un hijo una mención especial a naizen que como organización trabajáis para mejorar la vida de los niños y niñas

y un gracias a quien de forma generosa hace tan solo un verano me acercó a la realidad de su hija y convirtieron un objetivo
ético y moral en un compromiso político y personal nada más muchas gracias eskerrik asko rojo andrea elkarrekin podemos arana andrea zurea da hitza

ongi etorri bienvenidas a todas en este día tan importante para muchas de nosotras hace cincuenta años la clientela del bar

las excluidas de una sociedad machista y heteropatriarcal se plantaron ante los abusos constantes policiales y ante la discriminación existente ante los cuerpos diversos ante las identidades diversas y ante la libre expresión de la sexualidad

el principio de las manifestaciones que se dieron en los años posteriores en diferentes lugares y en diferentes territorios en euskadi se celebraba la primera manifestación del orgullo en mil novecientos setenta y ocho contra la ley de

y encuadrada en la semana de los marginados nacía el orgullo como herramienta de lucha por la diversidad sexual de todas las personas que componen nuestra sociedad

a la movilización social se han conseguido avances que demuestran la necesidad de seguir construyendo de forma colectiva

avances en materia de despatologización de la transexualidad de eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental o de aprobación de leyes que nos protejan de la discriminación

y económica de aprobación de leyes que reconozcan todas las identidades y cuerpos presentes en nuestra sociedad hoy es un día muy importante si cabe uno de los más importantes que podría vivir

en este orden defender hoy aquí la aprobación de la modificación del artículo tres de la ley catorce barra dos mil doce de veintiocho de junio

con esta modificación vamos a dar un paso muy importante

porque a través de esta modificación las personas transexuales por fin no van a necesitar un diagnóstico o un informe psiquiátrico psicológico o tratamiento médico

desde elkarrekin podemos aun así todos miramos con preocupación el auge de formaciones de ultraderecha y su irrupción por la complicidad de ciertos partidos en instituciones públicas que parecen empeñados en insistir en la propagación de discursos lgtbfóbicos

de los avances de los últimos años no vamos a dejar de reivindicar y luchar por nuestros derechos y nuestros sueños sueños que soñaste un día cualquiera tomando un café con aitzole y aingeru y que hoy se han hecho

hoy quiero poner voz a una mujer a la que admiro admiro por su trabajo su valentía y su lucha una mujer de la que he aprendido mucho actualmente portavoza en el ayuntamiento de donostia estas son sus palabras tu madre consume o consumió drogas durante el embarazo

eres una mujer a la que le gustan los hombres o las mujeres cómo no te quieres operar el pene

no te quieres poner tetas qué raro no a ti te gustaría más ser florista o cazar leones en áfrica pero tú sabes que nunca conseguirás ser una mujer verdad todas esas frases retumban aún a día de hoy en mi cabeza a veces pienso en ellas para un corto de humor quizá en un tiempo lo haga pero estas frases no son ficción son reales y han sido pronunciadas por profesionales de la salud por momentos me río

que doy alguien salta con que recientemente le han hecho la misma pregunta

que nadie utilizaba aquí a cuando en vez de llamarme por mi nombre me llamaban mariquita

o a cuando el tiempo se congelaba cuando planteaba a mis padres que era una niña y a los días me decían que no que no era una niña porque tenía pito

y como yo respondía que sí que si no lo era lo sería

hoy tenemos a familias que defienden a sus hijos e hijas para que les dejen ser eso mismo para lo que nadie pide permiso ni revisión las niñas y niños que sois desmontando muchos mitos y prejuicios por el camino tenemos aún hoy en día y muy

organizado y orgulloso hay cosas que han cambiado y hay cosas que siguen igual

sigue igual lo que hace que tengamos que pasar sistemáticamente por profesionales que nos diagnostican una enfermedad mental que solo se cura modificando el cuerpo

o hace que a muchas mujeres como yo las insulten o no las contraten sigue igual lo que hizo que justo mañana veintiocho de junio pero hace cincuenta años sylvia rivera mujer trans latina inmigrante trabajadora sexual y sin techo lanzaran en stonewall inn ese primer tacón contra los abusos policiales a los que era sometida sigue igual afortunadamente

para no seguir igual es un día histórico que mirando atrás en su yo de veinte años no hubieran imaginado un día para que las personas a las que se nos ha negado nuestra identidad nuestra dignidad

un día para decir alto y claro que no hemos elegido ser nada un día para que las leyes y muchas personas hagan ese cambio de mirada para con quien siempre

habéis sido un día donde las miradas gélidas se transformen en cálidas y ese día ha llegado

eskerrik asko y de muchas de las personas seguro que hoy nos acompañan me gustaría acabar recordando a todas esas personas que no han podido disfrutar de este avance a todas esas que nos dieron fuerza para seguir luchando a todas ellas les mando un abrazo

porque fueron somos porque somos serán y cierro con una frase de marta

la activista lesbiana que propuso hace cincuenta años salir a la calle y marchar con orgullo

ganas y acaba la libertad es algo que cada generación debe luchar para mantener

bere bidea bere gorputza eta bere bizitza erabakitzeko eskubidea izatea queremos que todas las personas puedan vivir

aceptadas o aceptarse en la maravillosa película pride que no hay nada peor que una causa perdida momentu hau baliatu nahi dut gaurko eguneraino ekarri gaituzten pertsonen

eta garaipena zuena dela hoy apostamos por reivindicar la autonomía sobre el propio cuerpo volver a reconquistarlo

que poder operarse o someterse a un tratamiento sea únicamente la decisión de cada una y cada uno y sea válida tanto esta decisión como no pero que todas podamos decidir qué simple y tan complejo al mismo tiempo acertar la libertad individual que nos hace crecer y enriquecer

nada más solo que me vieran a mí gaur

esta ley permitió que euskadi se situase a la cabeza del mundo en cuanto a reconocimiento de los derechos de las personas impulsando la primera unidad de identidad de género autonómica que ofrece un tratamiento integral y multidisciplinar en el año dos mil diez también fue creado el servicio

así como a sus familiares y allegados sino que también incluye la atención

también gracias a la aprobación del decreto doscientos treinta y cuatro barra dos mil quince sobre la documentación administrativa de las personas transexuales en el país vasco volvíamos a ser pioneros en poner en marcha una iniciativa tan necesaria como esta para el periodo de espera que

hasta lograr corregir la documentación oficial y tener un dni que refleje la verdadera identidad

mediante la aprobación y publicación del protocolo para los centros educativos en el acompañamiento

y también con la propia guía de atención integral a las personas en situación de transexualidad

ese mismo año el parlamento vasco siempre ha tenido presente la existencia de mujeres y hombres y niños y niñas transexuales dotarse del mejor marco jurídico posible para garantizar sus derechos vuestros derechos y atender a las necesidades específicas del modo más eficaz y una vez más el parlamento vasco ha escuchado y ha atendido vuestras necesidades y de las personas trans la citada ley catorce barra dos mil doce

en esta materia proposatu den aldarazpenaren arabera

zuek eta zuen gurasoak maitasunaren eredu zarete esta modificación legal venía siendo una reivindicación de los colectivos y asociaciones en pro de los derechos de las personas transexuales nos reclamaban

que vuestras situaciones fueran atendidas sin ningún prejuicio y sin la consideración de personas enfermas solo se modifica un punto del artículo

muy en cuenta nos coloca en el nivel de países como islandia el texto que se aprobará hoy es fruto de la colaboración con estas asociaciones con todos vosotros y vosotras hemos ido de la mano y en el futuro seguiremos trabajando juntos y juntas porque aún queda mucho por avanzar y conseguir tenemos que seguir construyendo una euskadi más respetuosa con la diversidad y en la que se reconozcan todos los derechos para todas las personas

mila esker es una necesidad y también es una obligación de todos los poderes públicos eskerrik asko

lehendabizi agurtu nahi dut hemen etorri diren pertsona guztioi como se ha dicho aquí la noción de transexualidad hace referencia

por la que el sexo que se supuso al nacer a una persona en atención a sus genitales no coincide

la transexualidad por lo tanto no es ninguna enfermedad no se puede diagnosticar no es ningún trastorno ninguna anomalía sino que forma parte de la diversidad humana por lo tanto no se

la identidad de género o sexual es lo que una persona siente como propia y expresa libremente reivindicamos como no podía ser de otra forma

de la personalidad humana reconocemos que hay que remover los obstáculos que sufren las personas transexuales

de la vida y reconocemos las discriminaciones que aún persisten en nuestra sociedad por la distinta orientación sexual o de identidad de género

en la ley actualmente vigente la ley catorce barra dos mil doce de veintiocho de junio de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de las personas transexuales no hay más que leer la exposición de motivos y esto queda absolutamente claro en el artículo tres se señala que a los efectos de las previsiones contenidas en la presente ley se entenderá como persona transexual

esté procediendo a la rectificación de la mención del sexo en el registro de acuerdo a la ley tres barra dos mil siete de quince de marzo

como la persona que acredite mediante informe de personal médico o psicológico colegiado los siguientes extremos

estable indubitada y permanente al respecto y que presenta una disonancia igualmente estable y persistente durante al menos seis meses entre el sexo biológico

como propia señorías no se trata de ningún diagnóstico y este grupo lo entiende así se trata de acreditar la circunstancia

a efectos de las previsiones que se contienen en la presente ley no se trata para nada de la identidad jurídica de la persona transexual para nosotros es una previsión absolutamente

repito de acceso a las previsiones y a los contenidos regulados en la presente ley se trata de acreditar de afianzar la voluntad

en el acceso como digo a las cuestiones que se regulan en esta ley por lo tanto quiero decir claramente que no es un diagnóstico de ninguna enfermedad

que diagnosticar se trata de acreditar una situación en la que la identidad de género

precisamente para que estas personas desde su absoluta libertad decidan por sí mismas lo que desean

ha pasado un año desde que quisimos abrir este debate y mejorar la propuesta que habíamos realizado socialistas y nacionalistas vascos este debate se pospuso a petición del grupo parlamentario eh bildu inicialmente y por el grupo popular después durante este año

durante la negociación presupuestaria a petición del grupo eh bildu y por la convocatoria dos citas electorales que han imposibilitado cualquier avance pero no podemos esperar más es necesario que este parlamento se pronuncie

y hacerlo desde la dignificación del derecho que tienen todas las personas que residen en euskadi a contar con unos ingresos mínimos desde ahí y no desde cualquier otro punto de vista la carga de la prueba sobre la eficacia del sistema está en los poderes públicos no en quienes se ven obligados a acudir

va esta proposición de ley el grupo socialista propone hoy que hagamos entre todos los grupos sin excepción el trabajo que se ha autoimpuesto esta cámara

de euskadi como país una de las principales fortalezas que ofrece nuestro autogobierno sobre este principio planteamos con esta reforma llegar

para más hogares haciendo más esfuerzo donde hay menores y pensionistas en riesgo de exclusión apostando por más inclusión y buscando más consenso es lo que tenemos que resolver en este pleno hoy para que en los próximos meses digamos como lo conseguimos

sino desde los mínimos que compartimos y hablo de los próximos meses sin más dilación

va a ser posible alcanzar el acuerdo global estamos convencidos de ello hay tiempo si hay convicción y voluntad y lo hay porque en este año ya hemos conocido diferentes posiciones de los grupos políticos de esta cámara no tendría que haber ninguna demora en esas propuestas

para que se traduzcan en enmiendas nos habría gustado haber adelantado

la fórmula de la proposición de ley haciendo uso de la potestad que tenemos todos los grupos la potestad que ejercitamos todos los grupos de impulsar las leyes

los socialistas nos comprometimos en las elecciones a abordar esta reforma para llegar a quien no llegue y lo necesite y para que nadie que no lo necesite se quede con un euro que no le corresponde y para que cada vez haya menos gente que necesite este apoyo porque consiga

atender sus necesidades este compromiso electoral lo compartimos cuando elaboramos el acuerdo de gobernabilidad a todo el arco parlamentario cuando se pidió en el primer semestre de la legislatura que hubiera una propuesta sobre la que trabajar cumplimos en tiempo y forma

que esta propuesta fuera de reforma integral del sistema y a la vez se propuso abrir la reflexión a distintos colectivos

a la mejora de nuestro modelo los socialistas no solo hemos participado en estas reflexiones en esta cámara sino que abrimos de manera paralela un foro en la fundación ramón rubial con distintos expertos que dialogaban entre ellos sobre la cuestión quedaba presentar la ley

pospuso hasta ahora su toma en consideración y que nuestra disposición es plena para todo lo que sea reforzar y ampliar derechos sociales para mejorarlos el grupo socialista tiene experiencia de confianzas para superar lo que parecen obstáculos insalvables para que nadie renunciara sus máximos y para establecer el suelo común

por mi grupo parlamentario como proposición de ley pero lo hicimos con un pleno aval jurídico y hoy seguimos siendo el único lugar de españa que tiene reconocida

una vivienda a la ciudadanía sin recursos para pagarla es lo mismo que pretendemos hacer si dentro de un rato este pleno avala la tramitación de la propuesta desde que la registramos hace más de un año hemos escuchado diversas opiniones tengo que decir que a los socialistas hay algunas que no nos ha gustado nada por excesivas o distorsionadoras pero hemos considerado que no era el momento de cruzar reproches ni subrayar diferencias porque en medio del ruido

una voluntad muy mayoritaria tal vez unánime de ir a lo fundamental a lo que hemos mencionado desde el principio más recursos para más hogares

hemos querido escuchar esa posición compartida de forma directa todos los grupos saben de nuestro compromiso y de nuestra determinación todos los grupos saben que los y las socialistas hemos querido conocer de antemano su visión las posibilidades de encuentro y de todas esas conversaciones hemos salido con la impresión

que podemos ofrecer una respuesta que corrija errores que plantee soluciones que ahora no se dan y se oriente para conseguir que con el derecho de la prestación

que tenga que acudir a este colchón ese será el gran éxito de esta reforma por eso el grupo socialista no quiere en este trámite de hoy hablar de las cosas en las aun que no nos hemos puesto de acuerdo lo que queremos recordar de dónde partimos y dónde proponemos ir partimos de un modelo de éxito como así lo entienden y defienden todas las organizaciones sociales con sus carencias con sus fallas pero es el modelo de referencia en el resto de españa lo ha sido para quienes como navarra y cataluña han abordado esta cuestión

no han podido alcanzar el punto de corrección y protección de desigualdades que sí hemos logrado en euskadi gracias al camino que hemos recorrido juntos en estas tres últimas décadas

contra la pobreza un modelo de éxito que no ha logrado sin embargo abordar nuevas realidades que se nos han venido presentando sobre todo

una crisis que los socialistas consideramos que no podremos dar por superada sin el rescate de quienes más lo han padecido y por eso hemos mirado a europa para avanzar en cohesión social creemos que hacen falta nuevas herramientas para

que permita ir adaptándose en cada momento a las unidades de convivencia distintas

que permita llegar donde no llega y hace falta que permita hacerlo especialmente en los hogares más vulnerables para la exclusión donde hay menores

donde hay víctimas de violencia en el ámbito familiar y especialmente por violencia de género

que se descargue de responsabilidad a las personas beneficiarias cuando se producen cobros indebidos y que se haga una valoración más pausada y proporcional de posibles incumplimientos con distintitos grados y donde la retirada de la prestación sea

como queremos reforzar de forma inexcusable los programas de inserción social y laboral

que no puede agotarse en esta ley porque requerirá también que se complemente con una reforma de lanbide que haga de ese organismo una herramienta

que está empezando a desplegarse el grupo socialista tiene la convicción de que estos objetivos son compartidos y que las herramientas para lograrlos están expuestas en esta proposición eso es lo que queremos que se valore

no es un cheque en blanco a nuestra iniciativa no es un apoyo ciego no es una renuncia a nada porque acordar no es renunciar acordar es fortalecer la gran apuesta de cohesión social

y el grupo socialista va a seguir con las puertas abiertas y la mano tendida para no despreciar ni una sola de las aportaciones vengan de donde vengan

hacer más sólido el suelo común hemos perdido demasiado tiempo

demasiado tiempo poniendo el foco en carencias e insuficiencias demasiado tiempo alimentando agravios nuestra ambición la ambición del grupo socialista es aún mayor es conseguir que nadie necesite ese colchón porque el resto de las políticas laborales y sociales garantizan que en todos los hogares ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas pero mientras eso llega proponemos dar un salto y estamos dispuestos a hacerlo con el conjunto de este parlamento por eso pedimos que se tome en consideración nuestra propuesta

y para la inclusión social es una buena ley que ha permitido que la sociedad vasca esté bien cohesionada y que los resultados del índice gini que miden la desigualdad de la sociedad desprendan resultados

estoy segura que también coincidiremos en que los diez años transcurridos desde la aprobación de la ley y la grave crisis económica sufrida nos hacen plantearnos

estos años de aplicación de la ley han puesto en manifiesto ciertas disfunciones

de cara a dar una mejor cobertura a las personas que peor lo están pasando de nuestra sociedad asimismo como hemos puesto de manifiesto en numerosas ocasiones

de esta importante ley requiere del máximo consenso posible de un debate sosegado y tranquilo fuera de periodos electorales y de discusiones partidistas

egiten gero irakurriko dizuet sareen sareak idatziz esandakoa la proposición de ley cuya toma en consideración debatimos parte del documento de bases para la mejora de la renta de garantía de ingresos presentado por la consejera artolazabal

el citado documento consta de tres partes diferenciadas una introducción un diagnóstico básico en el que se analizan el impacto funcionamiento y análisis comparado de la renta de garantía de ingresos de euskadi y una tercera con propuestas de mejora y cambio normativo

ahora unos comentarios de sareen sarea a quien supongo reconocerán su valía y trabajo en este campo

consideramos oportuna la mejora de la normativa reguladora de la garantía de ingresos

y por otro corregir las disfunciones observadas en su implementación

el informe presentado por el departamento de empleo y políticas sociales el de mayo de dos mil diecisiete nos parece exhaustivo bien construido técnica y documentalmente y útil como documento base para abrir el debate sobre la mejora del modelo vasco de garantía de ingresos nos parece primordial para poder mejorar el sistema de protección que tenemos partir de un análisis profundo de la situación actual de la rgi y creemos que el informe presentado por el gobierno vasco

estos datos reales y actualizados sobre la ley en vigor nos permiten ver ciertas disfunciones en su aplicación y mejoras necesarias para continuar siendo un referente de protección social e impedir que personas que lo están pasando mal se queden atrás

eginkizuna zedarritzea a continuación haremos un repaso somero a los cambios y mejoras más importantes que proponemos respecto a la normativa en vigor respecto a las prestaciones económicas de derecho se establece junto a la renta de garantía de ingresos la renta garantizada para pensionistas dirigida a las personas integradas en un núcleo pensionista que no dispongan de ingresos suficientes

la preocupación por la situación de las personas pensionistas es evidente y todos tenemos presentes

además en euskadi a las viudas con pensiones más bajas se les viene completando la pensión desde hace años y la mejora de las pensiones en el estado

para aprobar los presupuestos presentados por el gobierno de rajoy nos parece importante la diferenciación de la renta dirigida a las personas pensionistas porque evidentemente

no es el de la inclusión en el mundo laboral se redefine asimismo el concepto de unidad de convivencia a fin de equiparar en la medida de lo posible

a la convivencia real de las personas en el mismo domicilio asimismo

por circunstancias excepcionales se comparta domicilio sin pertenecer a una misma unidad a fin de mejorar la protección se modifican los requisitos de acceso y mantenimiento de las prestaciones económicas reduciendo a dos años el periodo mínimo de empadronamiento y residencia efectiva para las unidades de convivencia con menores o personas en situación de dependencia también se propone excepcionar el cumplimiento del periodo mínimo de empadronamiento y de presentar diversos documentos a las personas solicitantes de protección

para adaptar perfectamente la protección a las realidades diversas de la población se articula

dicho modelo se sustenta en una cuantía base determinada por el indicador de gastos mínimos comunes en euskadi y en unos complementos adicionales

violencia en el ámbito familiar discapacidad esta fórmula ha sido elaborada por expertos externos a los partidos políticos que presentamos la iniciativa

así como la visión de personas y entidades conocedoras de primera mano de la realidad a la que se enfrentan diariamente los colectivos de personas vulnerables habida cuenta que trabajan

se eliminan las suspensiones por incumplimiento de las obligaciones y se sustituyen por un sistema que refleja el compromiso de inclusión

o núcleo pensionista como consecuencia de la entrada en vigor de la ley de vivienda se elimina la prestación complementaria de vivienda la propuesta da

a la determinación de los recursos para el acceso a las prestaciones en particular en lo referente al cómputo del patrimonio de forma

en situación de necesidad en el caso de cantidades percibidas indebidamente y a fin de limitar el potencial impacto negativo sobre la poblacion beneficiaria los límites de prescripción petición avalada por muchos de los colectivos que trabajan para estas personas

y discutido en varias ocasiones en el parlamento la propuesta

del régimen sancionador con el objetivo de que sea un régimen más efectivo y aplicable a la realidad propia del sistema vasco de garantía e inclusión beraz

hobekuntza hauek ere número de miembros de la unidad de convivencia un adulto ahora recibe seiscientos cuarenta y cuatro coma cuarenta y nueve euros en la propuesta seiscientos cincuenta y nueve coma setenta y cinco unidad de convivencia compuesta por tres personas

novecientos quince coma cuarenta y siete euros en la propuesta novecientos cuarenta y seis coma cuarenta euros otro ejemplo cuatro personas en una unidad de convivencia de las que dos son adultas y dos menores en la actualidad perciben novecientos quince coma cuarenta y siete euros en la propuesta mil treinta y dos coma cuarenta

para no entrar en el fondo de la cuestión la legislatura pasada y esta también se han presentado varias veces proposiciones de ley

tenemos un texto articulado con mejoras respecto a la legislación vigente que nos ha de servir para negociar y acordar para conseguir entre todos los grupos parlamentarios

no dar trámite a esta proposición de ley en nada beneficia a la sociedad a la que tantas veces se apela desde la oposición darle portazo

la que tantas veces han criticado por los recortes y endurecimiento de requisitos que supuso respecto a la ley original de dos mil ocho debiendo recordarles una vez más que esta ley que ahora tanto defienden tampoco obtuvo el voto favorable de la izquierda abertzale

que no vuelvan a perder otra oportunidad los y las representantes de eh bildu ahora tienen la oportunidad de implicarse y trabajar por conseguir entre todos y todas

en sus manos también está avancemos hagamos propuestas concretas sobre el texto presentado por los grupos que sostenemos al gobierno estamos dispuestos a escuchar a acordar para entre todos y todas conseguir una ley puntera en protección social que continúe siendo referente a nivel estatal y a europeo

gonbidatuak egun on guztioi hoy estamos en un debate que dicen que solo es un trámite que la gestión o que lo técnico no es política pero lo primero que queremos decir es que eso no es verdad porque hoy debatimos el tipo de sociedad que queremos tener

así que nosotras sí vamos a hablar de contenido señora sánchez eta horri buruz hitz egiteko nahia clara eta anaren gorabeherak kontatuko dizkizuet

errealitate gordina nahia es una mujer superviviente de violencias machistas con dos niños que rompe con su agresor y se separa y se queda con sus dos niños pero sin ingresos porque lanbide le quita la rgi con esta proposición de ley

abandona a las mujeres como nahia esta ley nos invisibiliza a todas las mujeres en primer lugar porque no contiene informe de impacto de género y el trámite es casi lo de menos sin informe de impacto no se mide cómo esta ley afecta a más de la mitad de quienes la cobran y esconde el hecho de las prácticas arbitrarias de lanbide lancen a las mujeres un mensaje contradictorio denuncia que te vamos a ayudar pero luego no te ayudamos sin informe de impacto de género por ejemplo esto no se va a detectar nunca y no es que lo diga yo échenle un ojo al informe del ararteko en segundo lugar porque no menciona la necesidad de promover la conciliación y la responsabilidad y penaliza a la gente quitándole la rgi

todas vamos a pensar que el cuidado es una causa justificada porque es de sentido común pero

también lo dice el ararteko en tercer lugar porque esta ley desaparece el concepto de violencia de género del sistema de protección les suena

con olor a naftalina el de maltrato en el ámbito familiar y esto es inconcebible a la par de incoherente con su proyecto de violencias machistas pero sobre todo es un salto abismal hacia atrás niega de facto la existencia de las violencias machistas y en la rgi

en vez de ir a mejor van a ir a peor bienvenidas sean sin duda todas las medidas de discriminación positiva a quien lo necesite pero nunca jamás a costa de enfrentar o invisibilizar a unas para contemplar a otras

y lanbide tiene mucho por hacer lo hemos demostrado trayendo aquí iniciativas e interpelaciones constantemente y este camino que hoy se toma no es el que debería las mujeres nunca pero siendo la mitad de la población perceptora pueden

pero seguimos analizando la propuesta con el gran titular que mencionaba la señora arregi

por circunstancias de salud tiene que irse a vivir con su hija su yerno y su nieto y lanbide le corta la prestación al mismo tiempo ustedes expertas en vender humo sobre todo si genera voto sacan ese gran titular vacío

pero saben qué los pensionistas no son tontos y saben que aunque ustedes no lo cuenten casi veinte euros que van a ganar de más con esta propuesta que hoy se presenta es mejor quedarse con los doscientos cuatro que ganarían si no llevaran años retorciendo leyes y aplicando recortes

que además de suponer empeorar objetivamente sus condiciones les impide

sin pedirle permiso a lanbide y claro a saber cómo actuará lanbide yo desde luego no me fío y ojo hay que pedir permiso pero en ningún caso superar los noventa días fuera de euskadi porque si lo hacen en el plazo de un año por arte de birlibirloque lanbide te borra la residencia efectiva y adiós

pero además décimos que no porque esta ley demuestra que tenemos un gobierno que no sabe cómo vive una parte de la población en euskadi clara es una de esas madres a las que el pnv

y a la que lanbide se la quita convencidos de que tiene una pareja que debe de mantenerla económicamente cuando ella ha dicho por activa y por pasiva que la persona que aparece empadronada en el domicilio es una persona absolutamente desconocida pero quien le alquila la vivienda se niega a darle de baja con esta ley

muchas más dificultades porque está pensada para un mundo muy distinto al que en euskadi enfrentan miles de personas paso a decir algunas de ellas la primera tiene que ver con el cálculo de la cuantía porque la señora arregi se ha olvidado de decir

los gastos se cubren con cuatrocientos cincuenta y cinco euros por otro lado a esa cuantía ridícula le suma una serie de complementos que se traducen en dos consecuencias las personas que trabajan en lanbide no van a saber

nadie va a saber cuánto debería de cobrar y eso a quién beneficia desde luego a la gente y al derecho no pero además es que esos complementos

te las pueden quitar la ley no explica ni cómo ni cuándo ni por qué

en definitiva dejando como cuantía única y segura los cuatrocientos cincuenta y cinco euros siempre que tenga una vivienda tu sola porque si la compartes y tienes la suerte de entrar en una de esas numerosas excepciones que ha señalado la señora arregi

pero no solo hablamos de cantidades no con esta ley desoyendo a todas las expertas entidades y movimientos sociales que reclaman

para que accedan las personas jóvenes que si no fuera porque va a suponer un drama daría hasta risa me explico si ahora puede acceder cualquiera con más de veintitrés con esta ley

se llenan la boca diciendo que con dieciocho se va a poder cobrar pero solo si tiene más de doscientos cuarenta días cotizados y llevas un año viviendo de forma independiente

de ayudar a las personas jóvenes que tienen un porcentaje de paro escandaloso

se acuerdan ustedes de lo que pasó en el año dos mil once cuando se limitó a dos rgi por vivienda yo lo recuerdo como si fuera ahora mismo

a pesar de estar prescritos se les siguen reclamando a la gente dinero mal pagado por lanbide pero eso no fue lo único

los itinerarios a donde lo público no llega tuvieron que reinventarse y hacer

pasaron de uno o dos años a cuatro o cinco catastrofismo dirán ustedes porque siempre es lo que dicen no memoria y una firme convicción

podría seguir pero creo que esta idea ha quedado más que clara

política marcar como suficiente una prestación de ingresos mínimos que no llega a los mínimos de pobreza marcados por este gobierno además de una vergüenza es un reflejo de la voluntad política que están poniendo sobre la mesa

murrizketarik ez herritarren eskubideei murrizketa gehiagorik ez producto de esos recortes porque no se pueden llamar de otra manera

hay un estancamiento claro en euskadi de la pobreza severa que alcanzan niveles superiores al año dos mil trece que es el año más duro

no les da para pensar no creen que las soluciones igual no están sirviendo nosotras lo tenemos claro vamos a decir que no porque ustedes señoras y señores del pnv y del pse están obsesionadas con el control y se están olvidando de que la función principal de las políticas públicas

actúan ustedes como maroto de hecho pactan con el pp de maroto pero pretenden que no se les note y eso yo no sé si más pronto o más tarde

vidas que ustedes criminalizan cuando ponen la huella digital como identificador obligatorio en lanbide pasándose los mandatos europeos por el arco del triunfo

cuando utilizan conceptos del código penal para sancionar faltas administrativas vidas que criminalizan con el lenguaje que utiliza la proposición hablando de cooperador necesario de tipificación

aplicando estos elementos de una forma que podría ser cuestionable incluso desde la perspectiva de aplicación del código civil o penal vidas que criminalizan con el propio sistema sancionador que lo que busca es castigar a la gente no la inclusión social que es el fin último de esta normativa nosotras creemos firmemente

es fundamental en una administración responsable pero es que ustedes utilizan el invento de un fraude que no llega al uno por ciento

que en cualquier otro ámbito serían inconcebibles se imaginan que por olvidarse de sellar el paro te quiten el desempleo por tres meses y te pongan una multa de hasta doscientos euros este es el castigo que propone lanbide se imaginan que porque tu compañero de casa cobre en b un alquiler te pongan a ti una multa de quinientos euros y encima te impidan por ejemplo acceder a tu pensión de jubilación por un año

se imaginan que ayudan a un amigo a empadronarse porque se acaba por ejemplo de divorciar y este pide la rgi y te notifican a ti que te ponen una multa de hasta cinco mil euros o se imaginan que hace años

porque has cometido un delito esto textual es lo que recoge esta basura de ley esto es lo que quiere hacer lanbide y la verdad

de castigar a quien ha tenido la desgracia de caer en situación de pobreza o a quien ha elegido ayudar a otra persona a sobrevivir y yo me pregunto realmente se creen el derecho que tenemos reconocido

nunca se les ha pasado un plazo realmente son capaces de ver a los seres humanos que hay detrás de las cifras y de los expedientes realmente son conscientes de que lanbide no está legitimado

para limitar derechos para sobrecondenar o doble castigar a las personas

van a poder gestionar este caos de prestación que nos están presentando hoy dirán que no lo condenan dirán que se creen el derecho que hay que hacer sostenible el sistema pero yo le digo que los derechos

y con esta ley lo están destrozando los derechos no pueden estar regulados por una ley sin garantías una ley que de ciento siete artículos tiene setenta remisiones a desarrollo reglamentario

una ley que dice que el gobierno podrá poner requisitos nuevos causas de extinción cuantías y criterios de sanción total ya chapamos el chiringuito y nos vamos a casa porque el gobierno legisla por nosotras compañeras y esto no solo está feo es regalar la potestad normativa al gobierno es dar al gobierno un cheque en blanco para que haga y deshaga como ahora

es un cheque en blanco para seguir ignorando o desoyendo a las instituciones de control como este parlamento o como el ararteko al que ya ignoran día a día y para eso lo siento pero no van a contar con nosotras para recortar derechos ganados por la ciudadanía vasca conquistados por la lucha social señoras y señores del pnv y del pse y del pp a contar con nosotras en elkarrekin podemos hemos sido claras desde el minuto uno para dar pasos atrás no cuenten con nosotras insistimos en que esta era una oportunidad sin precedentes para virar a una propuesta más social ensanchar y poner en valor un derecho esencial para la ciudadanía como es el derecho

de ingresos para eso nos tienen disponibles y no tengan duda de que vamos a trabajar en las enmiendas pero esta base

y las alianzas que hoy se tejen son muy difíciles de dialogar hoy asistimos a la pérdida de una oportunidad sin parangón de mejorar la salud de euskadi

de la oportunidad de construir conjuntamente una sociedad más decente ustedes verán pero desde elkarrekin podemos no vamos a colaborar con la pinza de recortes que hoy como en el año dos mil once se vuelve a poner en escena

egiten gaituenera begiratu sabemos que hablarán de otros territorios y de nuestros resultados electorales yo he enumerado una serie de razones de peso que en la réplica me gustaría me rebatiesen dirán que son el gobierno del diálogo y que estamos de pataleta pero creo que tienen que pensar un poco en la técnica negociadora de darlo por hecho y querer al lado solo

cuando una casa tiene los cimientos jodidos y perdónenme la expresión no se pone en pie y esto

esto es lo que están firmando hoy con las excusas y colores que le quieran poner esto es lo que dice el pp que va a arreglar y con el que ustedes dijeron que nunca iban a pactar esta ley hoy dan otro paso para ahondar en la euskadi de dos velocidades dan un paso más para dejar desamparado a quien peor lo pasa y vaciar el sistema de protección de contenido y esa no es la euskadi que se demuestra y reivindica solidaria no es la euskadi de la apuesta por el bien común ni la euskadi que se compromete es solo una euskadi que pone parches

a quien no los tiene una que no está siendo capaz de prevenir para el futuro una que está lejos de ser la euskadi decente que queremos y necesitamos

esta proposición de ley contempla unos elementos positivos que no tenemos ninguna intención de negar

a los recortes vigentes una propuesta que presenta mejoras como anular la limitación temporal para la percepción de los incentivos al empleo pero que establece un límite adicional a esta prestación que parece una forma de financiar la propia medida

una propuesta que incorpora nuevos elementos como el indicador de gastos mínimos de euskadi que no sabemos cómo se construye

o que hace una apuesta declarada por las familias pero que no recoge mejoras necesarias para atender las situaciones de pobreza infantil una propuesta que limita

medida que dejará mucha gente fuera del sistema muchísima y que no responde a la realidad convivencial de las personas perceptoras de la rgi

con pocas o ninguna modificación en las condiciones de acceso o para corregir la falla que nuestro sistema tiene al ser uno de los sistemas con una edad más tardía de acceso al mismo

una propuesta que mantiene una excesiva centralidad en el empleo

que no responde a las mujeres condenadas a los cuidados que viven en absoluta precariedad

ni en tiempos en este parlamento acordamos que fuera el gobierno el que trajera el proyecto de ley no los grupos

de los grupos que recordemos fue presentada de manera insólita

se optó de manera unilateral por un procedimiento con muchas menos garantías que evitaba la presentación de todos esos informes que acompañan una ley y que impide que la oposición pueda plantear una enmienda a la totalidad y por tanto salvo que se llegue a acuerdos previos

supone sí un cheque en blanco baldintza honetan gaurko eztabaidarako elementu berririk ez dugunez

inguruan esandakoa gogoratzen dituzue begira la señora sánchez decía entonces a la señora garrido que había pervertido el debate sobre la rgi

parlamentarios tuvimos un consenso para no sucumbir a esas tentaciones electoralistas estoy de acuerdo la señora arregi pedía rigurosidad y seriedad al partido popular para no señalar a determinados colectivos y menos por su origen o procedencia

en aquel debate mencionaba usted que fue fácil llegar a un acuerdo porque al fin y al cabo los cuatro grupos teníamos como objetivo la defensa del sistema de protección pues precisamente aquel que no tenía ese objetivo es el que va a ser el que ahora quien facilite la tramitación

otra intención a lo mejor en vez de asumir el error y retirar esta propuesta de ley pretendían escenificar ese mito de la pinza pero esto ha hecho emerger la verdadera pinza de este parlamento eta egia da gaur ez da legea onartzen

que si pudiera la quitaría quien se lamentaba de que el pp utilizara los datos para crear confusión el que

que eso pondría en cuestión nuestra dignidad como sociedad non geratzen dira non geratzen dira

y genera un enorme prejuicio económico a euskadi esto lo decía amaia fernández

oyarzábal proponía una reforma que acabe con el efecto llamada y también hemos oído hablar aquí al señor alonso

que fichen como el resto de los trabajadores y tal ppk gaiaren inguruan dituen eskaerak argiak dira murrizketak agortuak diren paradigmak eta kontrola atzo bertan

el doble derecho no es a la inclusión laboral es a la inclusión no a la inclusión laboral y la inclusión está definida hace tiempo por decreto en esta comunidad autónoma

bueno vamos a ver señora kortajarena el veintiocho

usted pidió aplazar el debate no fuimos los socialistas y nacionalistas quienes retiramos la propuesta porque íbamos a perder eso no es así señora kortajarena usted salió a la sala de prensa

esperar para que su grupo tomara una decisión y también desde el grupo popular se pidió que se pospusiera el debate eso fue así

y eso quedó ahí plasmado en la rueda de prensa en otoño durante la negociación presupuestaria su grupo el grupo eh bildu

de calado con las cuales no estábamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma en febrero aprobamos el acompañamiento a la prórroga presupuestaria con aquello en lo que sí creíamos estar de acuerdo con la mejora en las cuantías con un mayor esfuerzo a colectivos de pensionistas después

que hemos tenido y desde luego todos los grupos estábamos de acuerdo que ese debate teníamos que alejarlo porque es lo que hemos intentado conseguir desde el principio alejarlo del debate electoral para que nadie intentara utilizar

esa cuestión para réditos electorales terminado todo este ciclo volvemos a estar aquí en el pleno para seguir dando pasos adelante

el apoyo suficiente para poder ser debatido en este parlamento es lo que queríamos que siga debatiéndose en este parlamento y si no lo conseguía que volviera al gobierno para que empezaran los trámites

los informes necesarios para que volviera como anteproyecto de ley por otro lado con el tema de la proposición de ley lo han repetido hasta la saciedad pero es que todos los grupos parlamentarios tienen derecho a presentar proposiciones de ley no solo tiene derecho

cuando la oposición lo presenta no pasa nada porque le falten informes jurídicos económicos el informe de impacto de género ustedes acaban de presentar proposiciones de ley y no pasa nada cuando lo presentan ustedes y no tiene los informes pero si lo presentan otros

no puede debatirse no puede hacerse como se ha hecho con otras leyes que se han aprobado y son muy buenas he puesto el ejemplo la ley de vivienda y se pone de excusa es que como no tiene el informe de impacto de género no se puede debatir si es que lo hemos hecho quinientos veces a lo largo de la historia en este parlamento

magníficas leyes que hoy son un ejemplo en españa por tanto

que no es así que no está correctamente

a ustedes les parece extraño que venga como proposición de ley y no le parece extraño al grupo eh bildu

en la negociación presupuestaria eso no le parece raro intenta meter ahí unas modificaciones que nosotros no estábamos de acuerdo pues no lo que queríamos era presentar una vez pasado todos estos plazos que hemos visto

ante la cámara la proposición de ley y si consigue el apoyo suficiente que podamos tener ese debate parlamentario aquí e iniciemos todo el proceso de enmiendas y señora guanche

a nadie esta reforma no excluye a las mujeres no es verdad no mezcle cosas para confundir no destroza nada

busquemos consensos y dejémonos de mítines vacíos y de rechazar trabajar y empecemos hagamos todos nuestras propuestas

cuanto antes y si ustedes quieren además podemos llegar a un acuerdo firmar todos los grupos y pedir

que habilitemos julio para poder empezar a presentar enmiendas en julio si ustedes quieren

nosotros estamos dispuestos desde luego creo que tiempo tenemos suficiente

si hay intención de llegar a acuerdos desde luego por nuestra parte vamos a poner

para poder conseguir una ley que mejore la actual existente y que consiga el mayor consenso posible y por eso pido que apoyen

guanche andrea zuk esandako gauzen inguruan bueno me decía la situación ha traído casos concretos las cantidades que iban

etcétera sí que por lo menos al final ha dicho que están dispuestos y que van a presentar enmiendas entonces le agradezco pero

ya pero es que no puede ser manga ancha para unos y estrecha para otros depende de quién lo defienda sí cuando ustedes acuerdan con el partido popular

son pues un compañero de viaje en el que han llegado a un acuerdo puntual para

en este caso el partido popular ha anunciado que se va abstener y se va abstener pero desde luego cuando nosotros presentamos la iniciativa era

cada grupo nos teníamos que retratar había pasado un año desde que se presentó hemos intentado avanzar no hemos conseguido avanzar hasta lo que pretendíamos pues bueno ahora tenemos el momento de hacerlo entre todos y todas y de conseguir

ley que se mejore esa ley con el mayor de los consensos posibles eta

que nos tenemos que dejar pelos en la gatera evidentemente pero que es imprescindible escuchar al que y a los que piensan diferentes

que tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos dejándonos pelos en la gatera y que más vale alcanzar uno aunque pretendamos cien pero siempre conseguir avanzar

la mejora de las condiciones de la ciudadanía penaz egia aitortu behar dut penaz ibilbide hau hemen amaitzen delako baina

bueno vamos por partes señora sánchez nadie dice que usted

lo que no está bien porque rompe la confianza que es la base del diálogo para llegar a acuerdos es acordar una cosa

hacer señora sánchez usted dice que esta ley no invisibiliza a las mujeres y yo de verdad que le quiero decir que hable un poquito con su compañera en andalucía

un escándalo tremendo porque vox ha decidido utilizar un concepto bastante similar a este en una situación bastante similar a esta

nosotras hemos dicho que los debates hay que dejarlo pasar y que hay que tenerlos sin duda pero también hemos dicho que esa parte igual se le olvidó subrayarla en el diario de sesiones que no hay negociación ni debate

y esta proposición de ley vulnera derechos entonces trabajaremos en las enmiendas no tenga duda no tenga duda pero esto

y escribiendo una nueva oportunidad que ustedes con este formato de presentación nos han quitado nosotras el año pasado no dimos la oportunidad de abrir el dialogo de continuar hablando sobre esta proposición de ley porque esta ley no recoge las aportaciones de los colectivos que vinieron a comparecer digan ustedes dos lo que digan porque ustedes no cumplieron en tiempo y forma el acuerdo que habíamos adquirido en diciembre de dos mil dieciséis

ustedes recuperan cosas en esta ley que de facto en la aplicación cotidiana de lanbide se han tenido que quitar porque vulneran derechos y tienen un montón de sentencias en contra

que son alegales o ilegales pero sobre todo ustedes dan con esta proposición de ley un salto hacia atrás y pretenden construir con pies de barro un derecho ciudadano y eso no se puede hacer así esta es nuestra enmienda en la totalidad les guste más o les guste menos consideren que tenemos más derecho o menos derecho de hacerlo

nosotras tenemos claro del lado de quién estamos y tenemos claro lo importante que es la renta de garantía de ingresos creo que lo hemos demostrado trabajando y presentando muchísimas iniciativas en este sentido creo que todas son conscientes del nivel de conocimiento técnico que tenemos sobre este tema y creo que saben que si estoy diciendo estas cosas no las estoy diciendo

si esta ley llegase a aplicarse así además de esto décimos que no porque no tiene la más mínima justificación que esta ley la haga pwc la presenten los grupos la paguemos todas y además la negocie el gobierno y además

señora sánchez ni nos llamen además de esto nosotras creemos un absoluto despropósito que hoy se negocie porque esto abre la puerta a negociar con quien dice cosas como que la rgi es un coladero sin control y le doy la razón a la señora kortajarena que me ha enmendado la señora

yo honestamente no me lo quise creer porque confiaba en toda la amalgama de discursos previos que había y que decía que con el pp en esto no nunca

dije digo digo diego y aquí no pasa nada pero la realidad es que esta ley de arriba abajo está llena de inseguridades jurídicas y de regalitos al partido popular y para eso

no cuentan con nosotras no contaban hace un año y no cuentan ahora es una visión profundamente criminalizadora de la pobreza y de la exclusión social una

buscarse la vida para salir adelante y nosotras creemos firmemente que las instituciones

trabajaremos con las enmiendas y en el proceso que se abre de ahora

pero insistimos para dar pasos atrás no van a contar con nosotras no contaron hace un año no cuentan hoy y no van a contar tampoco en el proceso de las enmiendas escucharemos a los colectivos también para que vengan a decir lo que tienen que decir respecto de esta ley que no es el documento de base sobre el que vinieron a posicionarse porque aquí si rompemos un acuerdo lo rompemos todas

ha sido sin duda unos años de mucho aprendizaje ha sido usted una rival magnífica también magnífica le deseo toda la suerte pero espero que quien venga
sepa a lo que se atiende porque seguiremos por aquí besterik ez mila esker eskerrik asko

jartzen daizkizuela eta hori horrela da y se ha incumplido las formas de cómo había que presentar esto y desde luego yo voy a intentar ser muy respetuosa porque no vengo a dar mítines

handia ematen duela se hablaba de construir consensos y yo quiero poner una y otra vez aquí que esos consensos

esas entidades que están aquí las entidades como usted mencionaba sareen sarea nos han planteado un consenso muy claro y aprovecho que está aquí el lehendakari porque él estuvo

reconoció la labor la aportación de las entidades del tercer sector a la cohesión social y a mí me gustaría pedirle al lehendakari que escuche a esas entidades que escuchen lo que tienen que decir estas entidades con respecto al proceso realizado a cómo se han recogido las aportaciones si se han recogido o no y al camino que hay que seguir de

dute hoy como decía debatimos la toma en consideración de la proposición de ley en relación a la modificación de la ley para la garantía de ingresos e inclusión social

modificada a través en el año dos mil once de los votos del partido popular y partido socialista ley que por cierto algunos

hoy aquí cuando en su momento votaron radicalmente en contra de dicha modificación

este grupo hubiera preferido la tramitación de esta modificación a través de un proyecto de ley obviamente estamos ante una iniciativa una modificación de una gran envergadura prioritaria y por lo tanto hubiéramos considerado más oportuno dicha fórmula

dejación de una responsabilidad y de los compromisos adquiridos en el propio calendario

por otra parte esta iniciativa obedece a los planteamientos y a las propuestas que ya la señora consejera nos presentó

en el año dos mil diecisiete en mayo de dos mil diecisiete por lo tanto creemos que hubiera dado tiempo de sobra a que este gobierno hubiera presentado el correspondiente y el comprometido proyecto de ley esta proposición de ley consideramos que presenta un texto ambiguo

insuficiente y absolutamente impreciso con sesenta y cuatro remisiones

tengo que decir que a lo largo de este año desde la presentación de esta iniciativa

no ha habido avances no ha habido contactos con el partido popular han sido escasos

contactos con algún grupo que hoy precisamente sea posicionado en contra de la tramitación de esta iniciativa de esta proposición de ley pero en este momento este partido como ya lo consideramos oportuno en la pasada legislatura consideramos oportuno que hay que abrir ya este debate

de la renta de garantía de ingresos del sistema de protección en euskadi y de lanbide pero este grupo el grupo popular reivindica una reforma

que la propuesta que se ha presentado no nos gusta y no va en absoluto en la dirección adecuada y también tenemos que decir señor lehendakari

usted tendrá que elegir porque el modelo de protección social que defiende el partido popular no tiene nada que ver con el modelo que hoy aquí

eh bildu y en esta legislatura ha defendido el grupo popular nosotros por lo tanto usted tendrá

y a quién escoge para recorrer dicho camino este gobierno tiene que saber que nosotros vamos a presentar nuestra propuesta alternativa con propuestas concretas porque no nos gusta su propuesta creo que eso ya es conocido conocemos

el modelo de protección en euskadi presenta múltiples deficiencias

queremos que se configure un sistema de ayudas justo que en el sistema

queremos que el objetivo del sistema de protección en euskadi sea la empleabilidad de las personas que reciben una ayuda social y en este sentido el sistema de protección no es un fin es un medio para la inserción laboral de las personas que están en el mismo queremos que una vez por todas

a la hora de buscar un empleo y que lleva a que esta prestación se convierta en un modo de vida queremos que se diseñen itinerarios personalizados planes de acuerdo a las características de cada persona presenciables y evaluables

para que los perceptores de la rgi reciban esos programas presenciales y que se evalúen

de gestión en la tramitación de las ayudas sociales y queremos claro que queremos

para detectar situaciones irregulares y de fraude que persisten que por cierto no sabemos en muchos casos cuáles son porque no están lamentablemente

estos eran los retos señor lehendakari o son los retos

y trascurridos tres años de legislatura ninguna de las dos se han puesto en marcha

a la hora de abordar una reforma en profundidad lo podía haber hecho con

cosa que no han hecho y han perdido una oportunidad el partido popular le va a presentar propuestas concretas y esperemos que este parlamento y los grupos que están representados en esta cámara las miren con detenimiento por lo tanto plantearemos los cambios necesarios para configurar

justo un verdadero sistema de protección justo y de ayudas sociales justo eficaz y eficiente y como he dicho antes que tenga como fin la empleabilidad y que desde luego esté a la altura de las expectativas de los ciudadanos vascos de una sociedad solidaria pero que hace un esfuerzo

tienen que estar aquellos que realmente lo necesitan y el sistema tiene que conseguir que esas personas tengan una oportunidad en su vida y se inserten en el mercado laboral y yo dicho esto también quería aprovechar para desearle lo mejor a la señora

a lo largo de estos diez años que además hemos compartido los diez años yo creo que

al acuerdo y también ha sido fácil cuando hemos estado en desacuerdo porque creo que si hay una cosa o cuestión que le caracteriza a la señora arregi

el desacuerdo y ha sido una buena compañera y en ese sentido le deseo lo mejor en su nueva andadura besterik gabe ondo izan

gracias señora presidenta señorías representantes del sector comercial gobierno desde el grupo popular estamos satisfechos porque hoy veintisiete de junio de dos mil diecinueve tenemos aprobada

establecimientos comerciales y no es poco como dice la disposición final tercera de esta ley entrará en vigor

en breve si hace un año y recordemos el debate de catorce de junio

nos dicen que hoy veintisiete de junio de dos mil diecinueve estaríamos en esta fase con una ley de ordenación territorial de grandes establecimientos

aprobada por unanimidad y que yo creo con un amplio respaldo del sector hubiéramos dicho que era una utopía los previos a esta realidad y no utopía porque ya se ha ejecutado es que la sentencia judicial de septiembre de dos mil quince

sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y equipamientos comerciales que imponían

equipamientos comerciales sentencia que decía que cualquier limitación o restricción

con rango de ley segundo decía que la introducción de limitaciones superficiales a la implantación no puede obedecer a razones exclusivamente comerciales y mercantiles que como tales están proscritas por la directiva europea de servicios la ciento veintitrés barra dos mil seis y también por la ley diecisiete barra dos mil nueve

y servicios y su ejercicio y en tercer lugar y no menos importante decía que dichas restricciones deben observar la triple condición de no discriminación necesidad y proporcionalidad con estos mimbres

que lo que procedía para cumplir la sentencia era y es aprobar un texto legal desde la perspectiva de la ordenación del territorio y aquí estamos con la amable colaboración de todos ustedes pues acabamos de aprobar como les decía la ley de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales parece fácil dicho así pero el trabajo ha sido intenso el gobierno no terminaba de comprender que era imprescindible aprobar un texto legal fue

ya a principios de esta legislatura nos habló de la necesidad de modificar la ley de actividad comercial que era la ley que teníamos concretamente el artículo trece la implantación

y ya hace un año el catorce de junio como les decía en esta cámara en la enmienda de transacción que se firmó aprobamos que el gobierno

pasado el tiempo e interpelado el gobierno en diciembre sobre esta modificación vimos que había disposición a hacer una ley pero que el trámite del gobierno y los plazos que nos anunciaban

aprobada en esta legislatura lo que nos animó y nos obligaba a presentar el texto elaborado por euskaldendak como una proposición de ley para llegar a un texto que nos en el objetivo inicial un texto legal con las garantías jurídicas suficientes determinar el marco jurídico general para la implantación

de acuerdo con la directiva europea y también como les he dicho con la ley

a las actividades de servicio y su ejercicio y la implantación o la ampliación de estos establecimientos comerciales serán objeto de ordenación territorial y urbanística específica en función del impacto en el medio urbano y natural el gobierno tuvo y ha mantenido una actitud

y vio en lo que podía ser una amenaza una pinza se llamaba en algunas ocasiones vio una oportunidad y de esa oportunidad que vio el gobierno estamos

en esta situación el grupo popular ya lo anunciamos en la interpelación que era la posibilidad la posibilidad era una proposición de ley para acelerar el procedimiento

que hemos aprobado esta ley como decía al inicio pues estamos satisfechos yo creo que no exultantes pero sí satisfechos todos hemos dejado cosas en el tintero

también los ayuntamientos en su acción tienen muchísimas cosas importantes que aportar y colaborar en el desarrollo de los núcleos urbanos y sus entornos no está todo hecho pero es verdad que esta ley supone un avance en lo que se refiere al urbanismo comercial en euskadi y me alegra

por sus promotores como la mejor que hemos tenido nunca para la defensa del pequeño comercio urbano y esto ha sido posible a la propia

muchas gracias también agradecer al departamento de ordenación y territorio y a la señora

en esta ocasión por su trabajo y sus desasosiegos que nos han llevado hasta aquí al señor grajales

agradecer al equipo de expertos que nos ha aportado su conocimiento su experiencia para redactar un texto complejo y con garantías suficientes esperemos que sean suficientes también agradecer a los grupos coparticipes de esta iniciativa y especialmente a sus portavoces la señora garcía y el señor casanova

haya llegado al orden del día y por último y no por ser los menos importantes al grupo popular porque

a poner chinitas en el camino a estos últimos los tendré presente

bien hoy los socialistas vascos llegamos a esta con la satisfacción de haber cumplido el objetivo de disponer de una ley de ordenación territorial de grandes establecimientos comerciales

hace algo más de un mes los socialistas señalábamos que hacía falta una norma

que ajustándose a las exigencias derivadas del derecho europeo y estatal y a la doctrina del tribunal de justicia de la unión europea y del tribunal supremo garantizase de forma suficientemente motivada las limitaciones a la implantación y ampliación

que esas limitaciones no obedeciesen a razones exclusivamente comerciales y mercantiles

observasen la triple condición de no discriminación necesidad y proporcionalidad pero no nos valía cualquier texto legal necesitábamos un marco jurídico

un marco que descansara en una serie de principios generales

que no consiente más limitaciones cuantitativas o territoriales que las que se basen en razones imperiosas de interés general

y sostenible y en el principio de coordinación interadministrativa

con garantías jurídicas ante posibles recursos en un tiempo record es debido entre otras cosas al trabajo previo realizado por el gobierno vasco con el avance de revisión de la modificación del plan territorial sectorial de creación pública de suelo para actividades económicas y equipamientos comerciales en lo que se refería a los grandes centros comerciales y con el encargo también en el mes de noviembre

de un texto legal para la regulación territorial de esos grandes establecimientos comerciales un trabajo que ha sido y que es un magnífico trabajo que nos ha servido de guía a la parte política por lo menos en lo que a mí respecta por la documentación que lo acompañaba y por la justificación jurídica de cada uno de los criterios que en aquel texto legal se manifestaban y lo dije en su momento

desde el ámbito de la ordenación territorial y que conservara el espíritu de consenso de dos mil cuatro en cuanto al modelo de actividad comercial en nuestras ciudades y en nuestros pueblos una regulación legal que protegiera

gracias presidenta una regulación legal que protegiera

con las adaptaciones necesarias al marco legal y jurisprudencial existente que promoviese el equilibrio territorial de la actividad económica que supone implantar y ampliar los grandes establecimientos comerciales y que además tuviese

máximas garantías jurídicas para la administración y los ayuntamientos

en este texto legal una de las claves del acuerdo logrado fue la constitución del grupo de tres expertos

trabajó la debilidad técnica de un texto de consenso desde posiciones y experiencias muy diversas casi antagónicas y la aceptación de ese texto como base de trabajo por parte de los grupos parlamentarios y no han sido pocas las dificultades que nos hemos encontrado en este proceso

damos las gracias a todas aquellas personas y entidades que han participado con sus aportaciones y comparecencias mi más sincero agradecimiento al señor juan ramón fernández torres al señor iñigo maguregi salas

que han compuesto ese comité técnico de expertos que nos sin dificultades también nos ofrecieron a los grupos parlamentarios un texto técnico de acuerdo de consenso sin el cual hoy yo estoy al menos convencida

de la ley que ha salido aprobada por unanimidad una ley importantísima una ley necesaria y bien sustentada jurídicamente también agradezco al gobierno vasco y permítanme que personalice en el consejero de medio ambiente planificación territorial y vivienda el señor arriola

desde el minuto uno a promover cuantas acciones desde el gobierno vasco fuesen necesarias para conseguir consensos para conseguir acuerdos parlamentarios

que se ha llevado a cabo por ese departamento y por la dedicación también de la viceconsejera de planificación territorial arantza leturiondo que ha estado en el día a día de este asunto y yo diría más en el minuto para avalar un acuerdo político y convertirlo hoy en un acuerdo importante en un acuerdo parlamentario importante y por último

de este parlamento y agradezco a todos los grupos parlamentarios su disposición al diálogo al diálogo además desde el mes de febrero si no recuerdo mal

en posiciones maximalistas que hubiesen impedido el consenso y el acuerdo y también por su trabajo político y parlamentario que nos ha permitido ir superando poco a poco

muchas de esas piedras que nos hemos encontrado en el camino gracias a los grupos porque nos han permitido cumplir con el objetivo de disponer una ley de ordenación territorial

muy buena técnicamente muy segura jurídicamente y espero que muy eficaz para todo el sector comercial que hasta ahora operaba de forma desregulada

de ahí que hayamos votado a favor de esta ley de ordenación territorial gracias eskerrik asko corcuera anderea elkarrekin podemos

hemos aprobado con el consenso de todas las fuerzas representadas en esta cámara una nueva ley de ordenación territorial

desde elkarrekin podemos valoramos positivamente el texto acordado cuyo objetivo fundamental es establecer limitaciones en cuanto al emplazamiento y al tamaño

de los municipios vascos además esta nueva ley servirá tanto para limitar la ampliación

en nuestros territorios como para que no proliferen ni se construyan más

proyectos como lo son los de hondarribia los de belartza los de garbera

etcétera consideramos que la implantación de establecimientos comerciales

y de manera indiscriminada va en contra del interés general de la sociedad no solo porque no favorece al comercio de proximidad y fomenta un modelo de empleo precario

atenta directamente contra la sostenibilidad económica social y medioambiental de los municipios donde se construyen amplían o implantan

era y es una demanda de los diferentes agentes del sector comercial y defiende los derechos del comercio local además de tener en cuenta

porque se trata de evitar lo máximo posible la construcción de nuevas carreteras así como el incremento de los desplazamientos forzados en automóvil

que provoca en muchas ocasiones para elkarrekin podemos es imprescindible

a nivel urbanístico medioambiental y económico por lo que si bien de una ley que da respuesta a problemas concretos que llevaban tiempo sin resolverse hay que seguir trabajando e impulsando medidas que garanticen también la protección y mejora

en los centros históricos hay por tanto muchos más retos que abordar en el sector comercial y seguiremos desde nuestro grupo parlamentario trabajando

que fuimos nosotras quienes registramos junto con los grupos de la oposición una iniciativa en diciembre ante la inacción del gobierno y de los partidos que lo sostienen

al vacío legal existente hay que recordar que llevamos más de tres años sin ningún límite legal para restringir la apertura y la ampliación de grandes establecimientos comerciales con lo que ello supone de inseguridad

esta nueva ley ahonda en la necesidad de regular la distribución de la oferta comercial tomando como referencia cinco criterios una ordenación del territorio adecuada

la protección del medio ambiente la necesidad de garantizar la accesibilidad de toda la población y por supuesto

además esta ley cumple con todos los condicionantes que establece la unión europea

a la garantía jurídica creemos que hemos hecho todo lo posible durante este proceso de negociación y de elaboración de la misma ley para que así sea en definitiva gracias a los grupos de la oposición y a la iniciativa de elkarrekin podemos

y protegerá al comercio local así como la sostenibilidad del medio ambiente y por supuesto el prototipo

de gran centro comercial en la periferia de los núcleos urbanos en euskadi como

no serán en ningún caso con esta nueva ley el modelo a seguir dentro del sector comercial

agradecer por supuesto el esfuerzo del resto de parlamentarias de otros grupos porque este texto el mejor posible es un pequeño paso y parte de su importancia para nuestro grupo radica en que hemos llegado a ese consenso porque

unanimidad hacemos a esta ley la hacemos más fuerte y por supuesto más garantista a la hora de aplicarla por supuesto también agradecer la valentía

dentro del sector y gracias a la labor que realizan las asociaciones de comerciantes

y sin ellas esta ley no hubiera sido posible seguiremos en cualquier caso trabajando seguiremos peleando porque hoy toca celebrar durante un rato si bien
hay que mantenerse alerta y vigilantes porque nos queda mucho trabajo que hacer milla esker eskerrik asko garcía anderea eh bilduren ordezkaria

más o menos hay acuerdo hay acuerdo en la votación y en gran parte del espíritu pensaba que me iba ser muy difícil ser original

porque seguro que nadie me da jabón y me cita a mí mismo luego la señora arregi me ha citado cambiando algunas cosas pero bueno me ha quitado hasta el punto

pero decíamos ayer más concretamente en marzo de dos mil dieciséis legebiltzar honetan denok garbi baldin badugu posiblea dela eta legezkoa dela

cuando desapareció la salvaguarda que impedía la nueva

empezaron a florecer como champiñones proyectos concretos que hubieran llenado todo nuestro territorio especialmente en algunos territorios como el de gipuzkoa de nuevos grandes centros comerciales creando un gran problema no solo en el sector del comercio sino en la ordenación territorial transportes medio ambiente

lana una persona que puede generar confusión porque rodea tanto con tal manto de pasión que puede que a veces no deje ver el profundo conocimiento técnico que tiene sobre estos temas que estamos hablando y sin cuya pasión y conocimiento difícilmente

murrizketak ezartzeko baina jarraituko dugu lanean eta pentsatzen dugu agian topatuko ditugula hemos llegado a esta ley a través de un acuerdo en el cual hemos incluido a los grupos el que apoyan al gobierno desde luego esta ley no estaría aprobada no existiría si no

por parte del colectivo de euskaldendak y los grupos de la oposición no la hubiéramos traído aquí

negociación y del diálogo con el gobierno lo lógico sería decir que hemos tenido que rebajar algunas de nuestras expectativas y eso es así eso ha sucedido pero también hemos incorporado

de que no toda la razón y no todo el conocimiento esta siempre de nuestra parte y hemos podido incorporar también esa parte de razón y esa parte de conocimiento que estaba fuera de nuestro grupo o fuera de los grupos promotores

la ley que se aprueba hoy es en términos generales mejor que la que se presentó en diciembre fundamentalmente

y de otros elementos que le han dotado de mayor precisión y seguridad jurídica lo que no quiere decir que el anterior no la tuviera pero es mejor aun así hay algunos aspectos concretos en el que fruto de ese necesario acuerdo o necesario acuerdo que hemos buscado para dar más solidez

nos hubiera gustado restringir aún más el número de metros a partir del cual se considera

este tipo de implantaciones nos hubiera gustado buscar más restricciones también a la implantación en los polígonos

en cuestiones técnicas nos hubiera gustado una ley quizás algo más exigente pero nos podemos conformar porque esta ley además de su calidad intrínseca tiene el valor añadido del acuerdo

y de entiendo recibir a partir de ahora el apoyo y la protección unánime de los grupos presentes en esta cámara gustatuko litzaidake eskatzea koherentzia

defendatzea mi primera reunión como parlamentario y yo no me voy pero puedo contar también una anécdota fue precisamente con el grupo de euskaldendak y estábamos hablando de la ampliación de horarios a través de la creación de zonas de gran afluencia turística y se había creado una plataforma yo llevaba aquí unos pocos días en el parlamento y bueno ahí me echaron a esta primera reunión

hay que tapar un hueco que tenemos ahí una falla que tenemos ahí que nos puede generar problemas no se tapó por parte del gobierno en su momento nos generó unos problemas pero hoy

por turno y probablemente también por haber sido el último en haber llegado a este debate

en definitiva a esta tramitación que para mí ha durado apenas quince días quince días en los que los del comercio nos hemos

en urbanistas a la velocidad del rayo y para cuando hemos querido darnos cuenta ya estamos aquí

le he oído al señor martínez quejarse por la tramitación exprés de la ley de policía que ha durado más de un año le he oído al señor estarrona quejarse de lo limitante del reglamento de la falta de idoneidad de hacer comparecer al uno al otro o de limitarlo a un solo día y saben quién me ha venido a la mente les gusta el cine roy batty recuerdan

al señor martínez y al señor estarrona y me han entrado unas ganas tremendas de decirles aquello

no he visto naves no he visto rayos pero he visto estirar el reglamento hasta orión

he visto esas mismas enmiendas llegar cinco minutos antes de empezar el debate por mail y con el debate empezado en papel tela y todo esto como ha dicho la señora lópez de ocariz formal formal y sin rechistar que para eso

porque aquí todos nos vamos poniendo la medallita yo no lo voy a hacer pero la auténtica muñidora de este texto y hay que reconocerlo de este texto que hoy sometemos a la consideración de sus señorías

y también me quiero referir al letrado al señor pagazaurtundua

también hemos hecho cosas mal y hay que reconocerlo no haber contado con los municipios y sus representantes en una ley

sobre sus ayuntamientos es imperdonable es

lo asumo por otra parte también creo lo decía el señor casanova que si bien damos un paso adelante tengo la sensación de que en esta cámara no acabamos de definir cómo ayudar

cuáles son a los retos a los que se enfrenta a día de hoy

esta medida dificultará la implantación de nuevas grandes superficies en lo que nos ha permitido la ordenación del territorio

esta ley va a ayudar a que no se ocupen nuevos espacios pero mucho me temo que tampoco va a ayudar a regenerar

y que tanto lo necesitan queremos necesitamos un comercio equilibrado y fuerte capaz de ofrecer empleo de calidad en una sociedad cambiante

y a revitalizar nuestros pueblos y ciudades pero para bien o para mal me tremo que esta ley no va a influir en los nuevos usos de las personas a la hora de relacionarse con el comercio

tengo la sensación de que a veces en esta casa matamos las moscas a cañonazos pero si sirve de algo por poco que sea